porque recientemente el ayuntamiento de durango emite un mensaje alarmista a los medios de comunicación alertando de la mala calidad del aire

este mensaje de preocupación por la calidad del aire se dio a conocer en una rueda de prensa

sin haber sido contrastado previamente con las instancias competentes en materia medioambiental y de salud instancias que a nuestro juicio entendemos que en una situación de riesgo evidentemente para la salud deben ser las primeras en ser advertidas en cualquier tipo de situación

insistió inicialmente en responsabilizar al gobierno vasco de no haber gestionado la situación medioambiental

y a los indicadores de benceno así como de cuestionar el trabajo realizado por el equipo de profesionales

consta que además hubo recientemente una reunión entre los representantes del departamento de medio ambiente

y la mancomunidad durangaldea al hilo de todas estas cuestiones sailburu

las inversiones la gestión todas las medidas implementadas en la comarca de durangaldea hasta la fecha cuál es la valoración que hace el departamento
de la consejera arantxa tapia sobre la calidad del aire qu ese respira en durango eskerrik asko eskerrik asko

ahots batzuk hori luzatu izan duten arren y antes de entrar a analizar cualquier cuestión así como los protocolos de trabajo que se han venido

años quiero dejar bien claro que la calidad del aire en durango y en su entorno es buena

ni riesgo para la salud del entorno de la población del entorno duela bi hilabete durangon piztutako kezkak eta zalantzak behin argituta

decir que no hay médicos no sirve de excusa hay que atender a la gente porque la gente se está sintiendo desatendida

con lo que eso quiere decir y eso conlleva en algunos casos además hay que invertir en salud pública porque los sistemas de rastreo han comenzado a verse desbordados creo que tenemos que atenernos estrictamente a las recomendaciones del centro europeo de control de enfermedades porque no lo hacemos ni al definir quién es un contacto

analicemos bien siguiendo ese criterio dónde y cómo se producen los contagios no puede ser que seamos el único lugar del mundo donde los contagios sobre todo se produzcan o en casa o en el bar ampliemos el foco

en los centros de trabajo en el transporte público en las escuelas en las universidades y tomemos medidas medidas muy concretas y medidas muy estrictas

más personal en la atención primaria para no desatender lo que no es covid para atender mejor el covid para intentar que no se colapsen los hospitales es crucial la atención primaria

llevamos diciendo muchos años y desde luego insistentemente en los últimos meses y planteemos planes serios para ayudar a los sectores que están sufriendo para ayudarlos ahora

todo eso señor urkullu es responsabilidad de su gobierno por eso le ruego que actúe

y la salud la salud y la economía herritarrak ongi informatuta egon behar dute gardentasunez

osasun publikoa eta osasun ekonomikoa bermatzea dagokigu usted nos pide medidas drásticas nuestras medidas son las más drásticas del estado aunque nuestra situación no sea la peor pero no es consuelo lo vengo diciendo estamos siguiendo la evolución día a día y adoptando medidas con el aval de las autoridades sanitarias

nos corresponde garantizar un equilibrio nos corresponde garantizar la salud pública

y así lo vamos a seguir haciendo mi valoración es que nos hallamos en una situación grave de preocupación por el tensionamiento al alza que tenemos que seguir adoptando medidas

hace un par de días en esta cámara el consejero de turismo comercio y consumo comparecía para explicar las líneas estratégicas de su departamento y entre esas líneas planteaba la estrategia en dos fases

en la que implantar medidas para mantener la actividad económica para mantener los empleos de los sectores del turismo del comercio y de la hostelería y una segunda fase tras superar la crisis sanitaria de recuperación de dinamización de los sectores del turismo del comercio y de la hostelería sectores que por otra parte resultan de los más afectados por las medidas que se están implantando

contra la expansión del coronavirus y también nos comentaba el consejero en su momento la necesidad ante una situación grave que están pasando

con una caída de las ventas en el comercio del veintidós por ciento en el segundo trimestre de dos mil veinte con una caída de la hostelería del sesenta y tres por ciento en la facturación del segundo trimestre y también con una menor una disminución de la entrada de turistas en euskadi

esa situación requería una serie de medidas que se estaban implantando y que se iban a implantar una de ellas nos comentaba era

bono denda una iniciativa que además era institucional

eudel y era además un acuerdo que estaba apoyado que estaba consensuado y que estaba participado por los sectores del turismo y del comercio y

por parte del departamento de turismo comercio y consumo va a tener una disponibilidad de cinco coma siete millónes de euros para su puesta en marcha porque se espera un impacto económico de veintiséis millónes de euros y ante esta iniciativa en concreto de los bonos

los socialistas vascos queríamos saber consejero cuál es la valoración que hace a día de hoy de esta iniciativa por un lado pionera por un lado además que se va a poner en marcha de manera inmediata y queríamos conocer cuál era su valoración

gracias señora presidenta lehendakari consejeros consejeras señorías gracias señora corcuera por su pregunta

cambiante de una gran incertidumbre y en el que es necesario tener flexibilidad

con agilidad y con el mayor consenso posible tanto con el sector como con las instituciones

por todas las instituciones gobierno vasco diputaciones forales las tres capitales y eudel y coordinado también con todos los representantes del sector de la hostelería y el turismo

y tienen como objetivo revitalizar los sectores más castigados

en los establecimientos de proximidad de nuestras ciudades pueblos y barrios

casi nueve millónes de euros cinco millónes en comercio y tres coma siete en turismo de estas cantidades la parte más importante la aporta el departamento de turismo comercio y consumo con los cinco coma siete millónes que usted ha mencionado

que esto pueda generar una movilización de unos veintiséis millónes de euros

pero en mi comparecencia el pasado miércoles ya les adelanté ciertas decisiones que habíamos adoptado respecto a los dos bonos el de turismo y el de comercio en el caso del bono comercio el plazo para que las empresas pudieran

puesto que recibimos un gran volumen de solicitudes en el último momento decidimos ampliar dos días más ese plazo

de establecimientos comerciales la distribución territorial de estas adhesiones se corresponde bastante con la demografía de nuestra comunidad en álava trescientos veintisiete un diez por ciento en vizcaya mil quinientos un cincuenta por ciento

un treinta y nueve por ciento las capitales han concentrado el treinta y cuatro por ciento del total y por ejemplo le pongo un ejemplo vitoria gasteiz el setenta y dos por ciento de todo el territorio alavés con lo cual

en el sector del turismo y la hostelería la situación es diferente puesto que está muy condicionada por las restricciones de movilidad

por eso las siete instituciones implicadas en este euskadi bono turismo hemos decidido seguir adelante

en coordinación también con el sector y por lo tanto vamos a retrasarlo y las adhesiones de las empresas se van a extender hasta noviembre y se va a ampliar su uso

comercio y consumo en esta crisis un plan de más de treinta millónes de euros en ayudas subvenciones y en otras medidas para el sostenimiento del empleo y la actividad mientras

pero no nos vamos a quedar aquí somos conscientes de que es necesario implementar nuevas medidas por lo tanto seguimos trabajando en estas nuevas medidas de rescate y en vías coordinadas y de consenso

a los sectores más necesitados contando con todas las posibilidades que nos ofrece el escenario actual ya estamos trabajando en una mesa interinstitucional en nuevas campañas de soporte y sensibilización en adaptaciones conjuntas y ante todo en una gobernanza real
en alianza con el sector muchas gracias eskerrik asko hurtado jauna

oleada una vez aprobado el nuevo estado de alarma nos parece que es más importante si cabe la gestión de medidas que desde nuestro autogobierno

a esta segunda oleada por eso nosotros quisiéramos saber si considera

las medidas adoptadas por su gobierno ante esta segunda oleada teniendo en cuenta la situación que tenemos quisiéramos saber si considera suficientes estas medidas para proteger tanto la salud pública
como para evitar el impacto económico y social en la vida de las personas en euskadi eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna erantzuteko

mantendremos el seguimiento permanente de la situación para adoptar las nuevas medidas que sean necesarias

y tenemos que continuar con el seguimiento valoración día a día con perspectiva sanitaria económica social y emocional reitero mi llamamiento a limitar nuestras relaciones a nuestra burbuja familiar

bai eskerrik asko lehendakari jauna nosotros creemos que en cierta medida ustedes no han aprovechado los

oleada para garantizar el mínimo impacto en esta segunda oleada

infectadas sino también para el propio control de la pandemia a nosotros se nos hace difícil entender cómo vamos a afrontar esta segunda oleada si estamos escuchando a médicos

y humanos parece además que la responsabilidad de los contagios está recayendo de manera

de la ciudadanía y no sobre sus condiciones de vulnerabilidad ante el virus o sobre las situaciones de riesgo que viven se ha puesto el foco

y que son necesarias pero a la vez nos encontramos con una falta de medidas importante en el transporte público las personas se tienen que desplazar a sus lugares de trabajo o de estudio

que faciliten esas distancias usted ha acabado implementando

que contradice en nuestra opinión lo que afirmaba hace apenas diez días el señor garitano nombrado

que afirmaba que este tipo de medidas no tenían demostrada su eficacia existe por lo tanto pensamos un cierto grado de improvisación y mensajes cambiantes

dinámica de la pandemia sobre todo a nosotros en este momento nos preocupa que junto a las medidas excepcionales para el control de la movilidad

que como le digo nosotros podemos respaldar es necesario implantar también medidas excepcionales para que esas restricciones no supongan un golpe en la subsistencia y en la economía

empezando además por los más vulnerables no comprendemos algunas declaraciones por ejemplo del alcalde de bilbao que afirmaba sobre las personas sin hogar que esta vez lo que está prohibido es el tránsito

no está en tránsito sino durmiendo nosotros pensamos que lo que hay que garantizarles es un lugar digno señor lehendakari nosotros podemos compartir

pensamos que precisamente para evitar ese debate las medidas para el control de la pandemia deben ir acompañadas de las medidas que garanticen que la población tiene garantizadas las condiciones

las medidas excepcionales que nosotros echamos en falta junto a las medidas excepcionales de control por ejemplo de la movilidad para controlar la pandemia besterik ez

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor hernández responsabilidad o responsabilizar a la sociedad no responsabilidad y responsabilizarnos cada uno de nosotros y de nosotras mismos y cada uno de nosotros y de nosotras mismos hacemos sociedad

responsable institucional le diré que hemos adoptado medidas reducir las agrupaciones de seis personas limitar los aforos al cincuenta por ciento reducir la asistencia en eventos sociales

prohibir la actividad en txokos y sociedades cerrar parques y jardines a las veintitrés horas o suspender las competiciones de deporte escolar y no profesional evitar la movilidad entre municipios y también con otras comunidades el viernes solicité

esta propuesta fue respaldada por once comunidades comunidades en las que ustedes también tienen responsabilidad de gobierno señor hernández

al día siguiente este lunes volvía a convocar el labi para presentar un decreto con medidas de prevención y medidas especiales de actuación

y actuación hemos ampliado la red de personas rastreadoras señor hernández hemos ampliado las camas uci

hemos garantizado el stock de material sanitario suficiente señor hernández están vigentes las medidas económicas y sociales fondo covid plan de choque con ayudas a sectores y personas más necesitadas

todo esto lo estamos haciendo desde la responsabilidad institucional hemos adoptado todas las medidas en un ámbito de gobernanza colaborativa con las instituciones competentes trabajando juntos este es para mí el sentido del labi que es un consejo asesor pero donde analizamos cada una de las medidas y las adoptamos de manera consensuada

su impacto y su costo en todo caso la mejor medida comienza como digo por uno mismo por la responsabilidad y el compromiso individual y también el colectivo analizamos nuevas medidas como la mayor limitación de actividad nocturna

la educación no presencial en los cursos superiores o decretar confinamientos más severos y tratamos de evitar esta última decisión que resultó tan dura en la primera oleada ante la falta de evidencias científicas claras porque esto es lo que no podemos olvidar

falta de evidencias científicas claras la falta de certeza sobre la vacuna la incertidumbre sobre la duración de la pandemia nos corresponde buscar un equilibrio que garantice la salud que normalice al máximo la vida ciudadana y mantenga la actividad económica como ocurre con muchas enfermedades tenemos que ir ajustando la medicación

viviendo y trabajando nadie tiene la fórmula ni en alemania ni en francia ni en euskadi y sabemos que la última alternativa es cerrar todo y confinar a toda la población

eskerrik asko legebiltzarburu andrea mis primeras palabras también

para condenar los salvajes atentados de terrorismo yihadista cometidos ayer en nuestro país vecino en francia y condenar obviamente también los altercados llenos de

se produjeron anoche en bilbao lehendakari jauna orain dela hamabi urte

se llama incumplimiento como usted sabe yo no estoy hablando aquí de derecho penal hablo de una ley aprobada como le decía anteriormente hace doce años que

leer compensar los olvidos la invisibilidad y la incomprensión sentidas por las víctimas y por ello

la verdad la memoria la dignidad y la justicia lo que está ocurriendo

cultura por poner un ejemplo en la literatura en el cine en la televisión

libros programas películas que ponen a quienes nunca han condenado a eta por cierto aquí sentados ante el espejo de la democracia pero en cambio en nuestras calles o en nuestra propia televisión en esta tierra proliferan también situaciones y actuaciones

y estoy hablando usted lo sabe de homenajes a terroristas que han cumplido su condena y que son homenajes que humillan a las víctimas o hablo de etb al servicio de todos los días de la tergiversación tergiversación de la memoria y la verdad sobre el terrorismo aquí en euskadi hablo también de entrevistas blanqueando el pasado de asesinos

hablo de documentales propios o ajenos silenciando las víctimas del terrorismo

o hace pocos días en basurto sobre la tortura policial que alimentan las tesis de las dos violencias

en euskadi es decir no hablo de derecho penal hablo de incumplimientos se lo vuelvo a repetir señor urkullu lehendakari jauna y por eso yo le quiero hacer la pregunta

doce años después de la ley vasca de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo eskerrik asko eskerrik asko iturgaiz jauna erantzuteko

lehenengo galderan esandakoa oraingo honetan gazteleraz condeno rotundamente los actos de terrorismo

y de la misma manera aprovechando también que hablamos de terrorismo condeno radicalmente los actos que ayer se produjeron en bilbao porque es un terrorismo también el que se practica de esta manera por atentar contra lo que es

el consejo vasco de participación de víctimas del terrorismo no nos ha hecho llegar a nosotros ninguna valoración en el sentido que usted apunta el programa de gobierno que es lo que a mí me corresponde

le aseguro que así ha sido y que así va a seguir siendo nuestro compromiso es el cumplimiento estricto de la ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo eskerrik asko

ya que no se lo hace llegar el consejo se lo hace llegar mi grupo político dice porque lo que le acabo de decir lo que le acabo de relatar es lo que estamos viendo y viviendo todos los ciudadanos en esta tierra por lo tanto no se tiene que acoger a la negación

al desconocimiento de lo que le digan otros usted vive también aquí en euskadi usted ve lo que le estoy contando usted presencia los ongietorris

usted ve las humillaciones a las víctimas un día sí y otro también usted y su partido político y el partido socialista

de gobierno reconocían que tienen pendiente el desarrollo de esa ley es decir es urgente que se desarrolle esa ley pero es imprescindible sobre todo

que se cumpla la ley y eso requiere una posición activa una posición activa de

eskerrik asko legebiltzarburu andrea señor iturgaiz usted me ha pedido una valoración

de la ley vasca de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo durante los últimos años las políticas de atención a las víctimas del terrorismo del gobierno vasco se han orientado al cumplimiento de ese objetivo así desde la dirección de víctimas y derechos humanos se tramitan una media anual de cuarenta y cinco expedientes de ayuda para la asistencia psicológica

además el gobierno vasco realiza una asistencia y acompañamiento personalizado

también contamos con dos instrumentos fundamentales para el buen desarrollo de la ley para el buen desarrollo de la ley el consejo vasco de participación de las víctimas del terrorismo que es un marco de un trabajo discreto fructífero y constructivo que merece

y también contamos con la convocatoria anual de subvenciones en las que participan las asociaciones de víctimas el gobierno vasco por otra parte mantiene una

con todas las asociaciones de víctimas del terrorismo en el estado español este es el ejercicio de nuestra responsabilidad ahora bien usted me pide una valoración usted ha citado los homenajes

es la justicia la que debe establecer si existe o no esa vulneración en todo caso respaldo

y reitero el déficit ético que supone la organización de estos actos se ha citado también un documental además entrevistas un documental emitido en etb pues mire comparto que es censurable que un documento

no recoja la opinión de las víctimas del terrorismo es cierto también

en todo caso insisto y reitero el compromiso del gobierno vasco con el estricto cumplimiento de la ley de reconocimiento y reparación de las víctimas del terrorismo eskerrik asko

buenos días a todas y todos andoni aldekoa de la torre eitbko zuzendari nagusi izateko proposatu zenuten urriaren hamairuko gobernu

guztiz legezkoa es decir a la pregunta de por qué se elige a esta persona la respuesta fue pues porque podemos

zurea da hitza pues la verdad señora mendia que
su departamento ni en público ni en privado hasta el día de hoy ha dicho nada sobre este conflicto pero el departamento de la señora tapia sí en varias ocasiones y luego nos referimos a ello porque lo ha hecho de una forma muy agresiva hacia las reivindicaciones y la actitud de los sindicatos ayer se anunció el despido de cincuenta y seis personas en alestis

que mandó a impedir que parte de la delegación sindical pudiera acceder al hotel donde se estaban dando las negociaciones a los de alestis les han echado por tener un buen convenio y a los de gestamp de matricería deusto les quieren echar por tener un buen convenio

hablando de otra manera por tener trabajo decente ese trabajo decente al que su gobierno dice aspirar y proteger

las empresas tiene una ett para emplear paradójicamente a los trabajadores fijos otra ett para los eventuales que no son tan eventuales porque llevan doce años

para las labores accesorias de carga y descarga pero estas empresas tienen un problema

con conciencia de clase con conciencia social y alto nivel de sindicación que les están impidiendo desarrollar esta pesadilla neoliberal que se quiere implantar en el puerto y su gobierno sí

y a favor de la precarización que están desarrollando la señora tapia en unas inaceptables declaraciones que hemos conocido hoy mismo pone toda la responsabilidad

que son precisamente los que están protegiendo el trabajo decente

comparte la señora mendia estas declaraciones cada vez que hay un conflicto laboral en este país

la única forma de mejorar los salarios de mejorar la estabilidad de mejorar los convenios es pelear

su gobierno sale sistemáticamente a decir que se toman rehenes que no es el momento que es una huelga política que las cosas hay que hacer de otra manera si su gobierno no hace nada más que criticar a los que hacen cosas para que se cree trabajo decente cuál es su actitud real cuál es su actitud real y por qué escabullen

sistemáticamente con la patronal begira hemen aukera bat daukazue

orales y son muy concretas y la pregunta concreta que usted me hacía para este pleno es qué va a hacer el gobierno ante los ataques que usted da por hechos contra el derecho a la huelga en el conflicto laboral que se está produciendo en el puerto de santurtzi y la respuesta concreta es que en la inspección de trabajo se está tramitando

existente en relación a este conflicto laboral es lo que nos corresponde no le puedo dar más detalles porque como le decía en el primer turno ni los tengo ni los debo de tener

lo que sí le digo es que este departamento vela por garantizar el derecho fundamental a la huelga esa es nuestra función y otra cosa distinta son las cuestiones que usted ha deslizado y que exceden del reglamento de la cámara se refieren al empleo digno y se refieren a la posición de este gobierno ante los conflictos laborales yo le puedo decir que este departamento se ha sentado

a las que ha sido citado en cada conflicto laboral que se le ha requerido

y trabajadoras de las mismas y le puedo decir que en cada conversación se le ha trasladado siempre lo mismo nosotros intermediamos cuando nos lo piden ambas partes y solo entonces porque lo que no hace este gobierno y no debe hacer ningún gobierno es pretender sustituir al instrumento más potente en la protección de derechos laborales que ha habido en la historia que es en la negociación colectiva y tampoco debería de hacerlo ningún partido político

y que una gran mayoría de esta cámara queremos sustituir por un estatuto de los trabajadores a la altura de las necesidades de este siglo veintiuno pero tan verdad como eso es que desde esa negociación colectiva y desde el diálogo social es como más y mejor en todas las conquistas laborales este departamento celebra y apoya cada conquista en esta materia esta semana hemos visto el acuerdo entre los pelotaris y una empresa de pelota hace apenas tres semanas veíamos cómo encontraba solución también

del metal en gipuzkoa hay a quienes les gusta más el resultado y menos porque creen que se podría haber logrado un mejor acuerdo pero hoy hay decenas de miles de trabajadores en gipuzkoa por convenio

una solución y espero que sea en términos de empleo de calidad como me lo ha oído decir muchas veces hace falta innovación hace falta diálogo y concertación y hace falta igualdad y estoy convencida que en el ánimo de quienes hoy están en huelga además de proteger su derecho en lo que contarán con nuestro departamento está también buscar una solución

siempre nos van a encontrar también eskerrik asko eskerrik asko mendia andrea

gracias señora presidenta señores consejeros señorías

sanidad y economía el mundo mientras sigue avanzando y sigue planteando otros procesos a los que debemos de prestar también atención

al complicado y problemático proceso de brexit

soy consciente de que la legislatura anterior fueron frecuentes los debates que tuvieron como objeto este tema pero en aquel momento es verdad que la situación era bien distinta a la que estamos viendo hoy porque se consideraba una posibilidad remota que ese proceso se realizase de forma no acordada sin embargo

el primer ministro británico boris johnson afirmaba que el reino unido

pero dice pero no a cualquier precio en fin que esto nos hace pensar que la posibilidad de un acuerdo

sea una posibilidad que hoy cobra mucha importancia cobra muchas posibilidades y por tanto es necesario por encima de la mesa las consecuencias

el treinta y uno de diciembre es decir prácticamente pasado mañana

ocupa el tercer puesto en el ranking de países a los que euskadi exporta por eso preguntamos a la señora consejera de desarrollo económico qué consecuencias prevé que tendrá para euskadi un brexit sin acuerdo

la gobernanza del acuerdo y la pesca que nos afecta también a nosotros directamente si para los primeros días de noviembre es decir la semana que viene no hay ningún acuerdo va a ser imposible que el día uno de dos mil veintiuno salga reino unido con acuerdo esa situación se acerca cada vez más y la posibilidad de una salida de reino unido sin acuerdo es cada vez más real la perspectiva para nosotros también es dura para el conjunto de la unión europea también para euskadi decía usted es el tercer mercado cierto el nueve coma dos de las exportaciones de euskadi van a reino unido

y hay ciento cinco implantaciones vascas en reino unido de todas maneras conscientes de esta situación no es que ahora vayamos a adoptar medidas sino que

comentar en dos mil diecisiete se constituyó la comisión brexit liderada por el lehendakari donde también el departamento que dirijo está presente abrimos una oficina de basque trade investment allí en londres para atender tanto al tejido

se ha puesto en marcha una herramienta de información en la página web

donde se ofrece toda la información y se hace un seguimiento detallado existe una herramienta de autodiagnóstico online para esas empresas que necesitan saber qué medidas tienen que adoptar y además desde el instituto vasco de finanzas y elkargi se ha puesto a disposición una línea de financiación de veinticinco millónes de euros

luego nuestras empresas ya están preparadas no es que no lo estén están preparadas para esa eventual situación no obstante el recorrido que puede tener esa situación que

unión europea y tendremos que hacer frente además de con estas medidas con alguna otra

solamente observo en su respuesta que prácticamente las medias que se han adoptado

de un brexit acordado simplemente

nueva y además nos va a perjudicar mucho más que antes igual convendría con cierta urgencia adoptar medidas específicas medidas especiales que protejan a las empresas no para un brexit no como las medidas que han mencionado ustedes sino

porque va a tener repercusiones tanto para las personas como para las empresas para las mercancías repercusiones importantes y creo que no debemos estar esperando a que llegue el

o no acuerdo mejor dicho creo que deberíamos de aprovechar el tiempo y

tomar medidas anticiparnos lo antes posible con medidas especiales para proteger a las empresas y a las personas de ese brexit no acordado gracias

akordioa ematen ez baldin bada ere bai y por ejemplo antes estábamos hablando

nuestros puertos están preparados para esa circunstancia

introducir la mercancía en caso de acuerdo y en el caso de que se produzca sin acuerdo

trabajarlo no solamente en nuestros órganos sino también en conjunto con otras actuaciones que tiene que llevar a cabo el estado por tanto estamos preparados

pero quiero insistir se está trabajando en los dos escenarios y nuestras empresas se han preparado para la eventual salida sin acuerdo y para la que esperamos que se produzca que es con acuerdo

bai señora consejera como usted bien sabe y la pasada semana en la comisión de desarrollo económico

la pregunta existe fruto del acuerdo

con una dotación de diez millónes de euros con cargo a los presupuestos del instituto vasco de finanzas destinado

a la toma temporal de participaciones en empresas vascas viables que puedan resultar afectadas por operaciones de desinversión de grupos extranjeros o por salidas abruptas de capital en empresas familiares es verdad que esta partida a este fondo

de condiciones para percibir estas cantidades económicas

y es que estas empresas participadas mantengan el nivel de empleo y las condiciones de la negociación colectiva y eviten el cierre de las plantas productivas en euskadi

la respuesta que nos dio en la comisión referida a que fruto de las consecuencias derivadas de la crisis del covid había encontrado su departamento o el gobierno vasco el momento de poner en práctica esta partida porque había según nos dijo otras prioridades

las deslocalizaciones permanentes que se están dando en euskadi

económicas derivadas de la misma y por tanto le formulo la pregunta cómo es posible que en estos momentos de crisis económica y de deslocalizaciones permanentes de empresas

la oportunidad para hacer uso de este fondo de capital riesgo eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

se ha analizado los impactos que tienen como consecuencia el covid diecinueve y se han realizado un total de nueve operaciones

en nueve empresas por valor de ocho millónes de euros por qué porque el fondo los fondos de capital riesgo que existen en esa sociedad pueden y han

no obstante ese nuevo fondo que se había acordado con elkarrekin podemos no se ha puesto en marcha se ha atendido desde otro lugar pero también le quiero adelantar que

de estos próximos días se podrá poner en funcionamiento este nuevo fondo con esos objetivos no obstante no porque este fondo no esté funcionando hemos dejado de atender a las empresas se han atendido las operaciones que han llegado y se ha conseguido poner en marcha esas nueve operaciones otra cosa distinta

ninguna operación pero yo creo que son aspectos diferentes pero no porque esos diez millónes

con elkarrekin podemos no se hayan materializado en un fondo ad hoc

porque no se haya materializado ese fondo hasta la actualidad no hemos dejado de atender a las empresas yo creo que es un elemento importante señalarlo en estos momentos eskerrik asko

gracias por la contestación en cualquier caso desde nuestro grupo consideramos que

que se hayan podido encontrar desde su departamento en relación con la participación en empresas en situaciones

su actividad consideramos que también se han dado situaciones que han sido

y que no puede repetirse es decir que se aporten ocho millónes sin evitar la deslocalización de la actividad productiva de las empresas es una práctica desde nuestro punto de vista no favorece el interés general ni el mantenimiento de la actividad productiva en este país solo si acaso

en los casos en los que corresponda consideramos que todas las aportaciones que el gobierno vasco realice para sostener la actividad de las empresas en el territorio

en el propio territorio de euskadi también el mantenimiento de los puestos de trabajo y también que el gobierno vasco tenga a su disposición la capacidad de toma de decisiones y de la recuperación de la inversión a posteriori y con ciertos plazos creemos que eso en muchas ocasiones no se pone en práctica por parte del gobierno vasco

debería de realizarse en cualquier caso instar a que este fondo de capital riesgo como usted ha mencionado se ponga en práctica porque en esta situación de crisis económica derivada del covid no creo que haya
oportunidades para poner en marcha y dotar a empresas en situación de crisis con estos diez millónes eskerrik asko eskerrik asko soto jauna

de crisis las atiende tanto en zonas como en empresas

y poniendo a disposición de nuestras empresas los distintos recursos que tengamos entre ellos los fondos de capital riesgo que son diferentes de lo que pueden ser subvenciones o actuaciones de prestamos en determinados momentos para hacer inversiones como son los programas gauzatu en el caso de subvenciones y prestamos

empresas y para actuaciones que vayan a llevar a cabo llevan siempre asociado el mantenimiento del empleo la no deslocalización bueno muchísimos requisitos como usted bien conoce

de capital riesgo son nuestras inversiones en esas empresas para hacerlas crecer para hacerlas más exportadoras para que un emprendedor pueda tener un camino y en ese sentido quiero señalarle que nada menos que ochenta empresas en este momento tienen participación del gobierno participación de los fondos de capital riesgo públicos

ese recorrido pero yo creo que son dos actuaciones distintas unas son para de tipo subvencional o de tipo prestamos para hacer inversiones y crecer

atenciones a empresas en crisis y creo que debemos ser rigurosos ustedes y nosotros en diferenciar cuáles deben ser los instrumentos que tenemos que poner a disposición de las empresas en función de su situación particular eso es lo que pretendemos hacer y desde luego
ese fondo acordado con elkarrekin podemos será una realidad antes de final de año eskerrik asko eskerrik asko

vale bai bueno señor azpiazu

dos semanas le formulé una pregunta oral que iba

que tuvo lugar la semana pasada pudimos intercambiar posturas

a esta cuestión también ayer con motivo de la modificación del punto de lectura única que nos trajo desde su departamento también

en cualquier caso consideramos que es fundamental tener este debate porque en los próximos meses va a ser un debate central y previsiblemente también en los próximos años voy a resumir mi intervención básicamente o voy a reducir mi intervención básicamente a tres ideas la primera de ellas es

que consideramos que prácticamente la totalidad de los grupos ha asumido y es que el endeudamiento es bueno dicho en unas palabras

es verdad que en los últimos años no todos los grupos políticos aquí representados

que la capacidad de endeudamiento fuese una herramienta necesaria para hacer frente a los procesos de crisis económica sí parece obvio que ahora mismo todos o prácticamente todos los grupos se han sumado a este nuevo credo

y de no limitar la capacidad de déficit en cualquier caso sí que nos parece que

abordar la capacidad desde el gobierno vasco de no limitar el endeudamiento y afrontar la crisis económica se tiene que hacer con varias perspectivas en primer lugar una de ellas tiene que ser la de liberar partidas presupuestarias de emergencia que permitan reforzar de forma inmediata los servicios públicos pero esto

desde la perspectiva de la reasignación de partidas exclusivamente es decir

recortes en determinadas partidas para poder mantener otras

mediante el endeudamiento porque lo que hemos visto en los últimos años en relación con la incapacidad de abordar el déficit sin límites ha sido pues la senda de austeridad que ha supuesto límites

en la atención primaria en las uci en el gasto público en sanidad y en educación y consideramos que es necesario recuperar los niveles de inversión por lo menos en términos porcentuales en sanidad y educación a los niveles de dos mil diez para ello hace falta una inversión pública muy

y para ello es necesario en estos momentos la capacidad de endeudamiento la política de austeridad de los últimos años ha supuesto la pérdida de vidas de manera innecesaria ahora fruto de la crisis sanitaria porque si hubiesemos dispuesto

necesarios ese escudo social obligado para poder compensar la crisis sanitaria vivida pues

hubiese existido en segundo lugar el sector público también debe liderar

económica y lo debe hacer incrementando el gasto pero sobre todo también gastando bien y no nos parece que asumir inversiones

o que estén pensadas para mantener una cierta malla clientelar vaya a aportar a que la inversión productiva en este país se mantenga

hay un dato en los cuadros macroeconómicos que ha dado su departamento que nos generan cierta inquietud y

público ustedes lo prevén en un tres coma cinco para dos mil veinte pero en un uno coma cinco para el dos mil veintiuno

para afrontar el consumo público y

que las administraciones no van a hacer la inversión pública necesaria para sostener la actividad productiva de este país o por lo menos que sea la administración quien lidere esta recuperación económica sino que lo

de la actividad privada por otro lado creemos que el incremento de las administraciones públicas ligado a lo que le comentaba

creemos que puede llegar a ser insuficiente es decir un dos coma seis del pib y luego un cero coma nueve pactado para las tres diputaciones

a la vista de las circunstancias que estamos viviendo ahora mismo con la segunda ola del covid y que eso puede poner en riesgo

mencionaban como posible recuperación desde el sector privado en los próximos años creemos que podemos encontrarnos con que esa recuperación no se dé y que por tanto

tenga que hacer frente desde se tenga que hacer frente desde las administraciones públicas

más valiente y más arriesgada el liderazgo por la recuperación económica porque percibimos que además de la recuperación desde el sector privado

el endeudamiento del estado central y también lo que tenga que ver con los fondos europeos en euskadi y creemos que esa no debe ser la fórmula teniendo en cuenta la capacidad de autogobierno que tiene

que el estado se vaya a un déficit del once por ciento y que luego tengamos las dotaciones del fondo europeo que llegarán cuando corresponda que lleguen si es que llegan no debería de ser la única fórmula que aborde el gobierno vasco a la situación derivada del covid y en tercer lugar la reforma fiscal necesaria

necesaria reforma estructural de la política fiscal además lo recogen en su acuerdo

en qué términos se realizará esa reforma fiscal pero a nosotros nos parece

que si recurrimos al endeudamiento pero la carga de las administraciones públicas

en los rendimientos del trabajo difícilmente saldremos de esta situación de crisis de una manera justa en el futuro y qué puede pasar si esa recuperación desde el sector privado no se da y además tenemos

que si no hemos hecho las transformaciones necesarias en la política fiscal no dispondremos de nuevas herramientas o nuevos recursos para dotarnos de más

y seguramente que la respuesta que desea porque estas reformas fiscales atenazarían

en este país pero es que las reformas fiscales que nosotros le planteamos fundamentalmente van dirigidas a las rentas más altas del irpf y también al impuesto de sociedades que se cobra cuando existen beneficios y hay empresas que a día de hoy todavía cobran

beneficios y ahí consideramos que el gobierno vasco tiene oportunidad de plantear medidas sabemos que la competencia para regular esta cuestión es de las diputaciones pero el gobierno vasco dispone de recursos para poder aplicar

que aporten justicia social al entramado fiscal de este país está la fórmula de los recargos para determinadas para determinados tramos

que podríamos aplicar y también está armonizar fiscalmente el tipo por ejemplo del impuesto de sociedades de tal manera que podamos hacer frente pero poniendo en aquellos que más tienen la recuperación económica y que esta salida de la crisis además de mediante el endeudamiento sea con una visión de justicia social desde el punto de vista impositivo porque si no dentro de uno años si la inversión privada no ha hecho frente a la crisis como ustedes plantean

tampoco desde la inversión pública que el gobierno vasco pretende hacer que en nuestra opinión puede ser escasa cuál va a ser la fórmula para poder salir

dentro de unos años si no disponemos de recursos para dotarnos financieramente o fiscalmente y por tanto es necesario hacer esa reforma fiscal ya y no dejarla para más adelante y con esto terminaría siempre instarle nuevamente a que abordemos

de empezar a hablar del presupuesto las posibles reformas fiscales necesarias en este país eskerrik asko eskerrik asko soto jauna erantzuteko jaurlaritza

gustu handiz gainera veo señor soto que usted insiste e insiste bueno pues yo tampoco tengo problema en responderle cuantas veces quiera no voy a proceder a explicarle y esta vez de forma espero que

y aquellas que tiene previsto tomar en un futuro inminente porque los instrumentos de economía pública a los que usted se refiere llevamos desplegando desde hace más

marzo perdón el gobierno vasco y concretamente el departamento que dirijo se ha enfrentado a esta crisis con todas las herramientas de las que disponíamos no olvide tampoco

tres días después de la declaración de emergencia sanitaria por parte del lehendakari lanzamos desde el instituto vasco de finanzas una línea de apoyo financiero a pymes dotada con veinticinco millónes

un nuevo programa presupuestario dotado inicialmente con trescientos millónes

autorizamos el cobro de la prestación por desempleo a los socios

o a un ere por razón de fuerza mayor debido al impacto del covid establecimos medidas urgentes extraordinarias de la contratación pública

y medianas empresas personas empresarias individuales y profesionales autónomos para el año dos mil veinte para responder al impacto del covid dotado con quinientos millónes

realizamos operaciones financieras de deuda por valor de ochocientos ochenta y cinco millónes de euros y hemos aprobado ayudas públicas ante las pérdidas económicas en los sectores de comercio y de la hostelería de los trabajadores y trabajadoras autónomos

parados no hemos estado conscientes de la gravedad de la situación que estamos pasando

siendo muy conscientes de que además de la grave crisis económica que vivimos

de relacionarnos y de actuar ante determinadas situaciones una crisis emocional que ha sido capaz de cambiar nuestros hábitos y nuestras rutinas y que ha hecho que todos en algún momento hayamos tenido inseguridades y miedos el covid es muy

crisis el gobierno también lo es que ha generado esta situación sanitaria y va a actuar en consecuencia más

en una segunda ola que hace previsibles unos meses muy complicados el escenario macroeconómico ha tenido en cuenta las previsiones realizadas por diferentes organismos en los peores meses de la pandemia en abril mayo y junio como sabe las previsiones de gobierno vasco contemplan la subida de un aumento del ocho coma nueve

señor soto no es inversión pública el consumo público básicamente es gasto de personal en el cuadro macroeconómico la del dos mil veinte es la mayor caída de nuestra economía de las últimas décadas y previsiblemente no retornaremos al nivel de crecimiento conseguido en el diecinueve hasta

en estos momentos el gobierno perdón se encuentra en pleno proceso de elaboración de presupuestos para el veintiuno el seis de octubre

las directrices presupuestarias que marcarán la confección de los mismos sin duda

un intenso reto para el ejecutivo son los primeros de la presente legislatura y vienen marcados por la crisis sanitaria y sus consecuencias económicas

y que no contemplan recortes en las políticas públicas señor soto espero que esto le tranquilice

cuantas aportaciones consideren para que las podamos analizar siempre en el marco presupuestario y competencial reitero

en esta misma sede lo comenté también en mi comparecencia

un importante impulso presupuestario en dos mil veintiuno

los sectores más afectados por los cambios de la demanda el impulso

y la proyección internacional de euskadi o las dedicadas a reforzar la nueva política financiera adaptada

todo ello con un esfuerzo claro en inversiones además de estos ejes los presupuestos recogerán una clara apuesta por las transiciones digital y energética el pasado quince octubre

a las instituciones vascas contar con unas cifras sobre las que elaborar nuestras cuentas

ya que lo expliqué en mi comparecencia la pasada semana en esta cámara las previsiones de recaudación para el dos mil veinte de tributos concertados se cifran en trece mil cuatrocientos once coma seis millónes de euros lo que supone una disminución del trece coma tres en términos absolutos

menos de lo recaudado en dos mil diecinueve el año que viene se espera

con la expansión económica prevista y así se estima que las diputaciones forales recaudarán

lo que supone un incremento del seis coma tres por ciento respecto a la recaudación dcr prevista para el año dos mil veinte en cuanto a las aportaciones de las diputaciones forales se ha acordado un importe de nueve mil seiscientos diecinueve millónes

menos que las aportaciones presupuestadas para el año dos mil veinte

es un escenario muy complicado lo gestionaremos con absoluto rigor y responsabilidad porque

habrá que pagarla evidentemente mañana por lo tanto deuda pública sí la que sea necesaria no hay ningún problema señor soto para cubrir todas las necesidades a los que tenemos que hacer frente ni más ni menos de la que sea imprescindible

ni para nosotros ni para nadie ni para las generaciones venideras vamos a tratar de que la deuda

por este parlamento junto a esto también conocemos las tasas de referencia acordadas el treinta de septiembre en la comisión mixta del concierto

con el gobierno de españa así el gobierno vasco cuenta con un límite

también critica usted el hecho de que no hayamos

los años pasados le tengo que recordar la ley de estabilidad que lo impide y que además ustedes rigurosamente y como deben hacerlo cumplen estrictamente en el gobierno de españa estas cifras que le digo señor soto

incurrir en un delito de mil setecientos dieciséis millónes de euros en dos mil veinte

en el veintiuno a esto hay que añadir la suspensión de las reglas fiscales por parte de europa lo cual nos va a permitir manejar estos márgenes con cierta flexibilidad

profundizar en este punto la unión europea sigue la estela que desde el inicio de la pandemia ha mantenido ya que siempre ha declarado su intención de huir de la austeridad

es bueno y necesario compartimos esta idea señor soto las instituciones europeas parece que también parecen haber entendido además el error que supuso su actuación en la etapa de la gran recesión lo que

ahora son tasas de referencia y el hecho de que no haya reglas fiscales estos dos años no implica que no se deba actuar con responsabilidad fiscal

volveremos a tener que recuperar la senda de estabilidad eskerrik asko eskerrik asko

muchas gracias señor azpiazu por las respuestas y sí efectivamente vamos a seguir insistiendo en varias líneas en primer lugar en que

ejercicio el del dos mil veinte teniendo en cuenta lo acontecido ayer como previsiblemente para el dos mil veintiuno

es decir que en relación con los gastos previstos antes de la crisis en la capacidad de las administraciones para incrementar el gasto incentivar la inversión pública esa es una interpretación que hacemos nosotros muy negativa de la política en relación con la capacidad de inversión

del gobierno vasco porque usted ha hablado de determinadas partidas que ya se han puesto en marcha

efectivamente pero ese dinero que se ha hecho que se ha utilizado para poner en marcha estos programas

económica derivada de la crisis sanitaria ha venido de una reasignación de recursos y por tanto

podría ser asumible y podría ser razonable desde la perspectiva de liberar determinadas partidas

incorporársele mayor capacidad de endeudamiento para dotar de mayores recursos en programas

básicamente lo que ayer le planteábamos respecto al tema de la política

no ha mencionado prácticamente nada y en eso sí que vamos a seguir insistiendo endeudamiento sí como usted ha dicho con el límite necesario y ajustado a las necesidades

este endeudamiento tendrá que ser asumido por parte de las generaciones venideras y no podrá ser en nuestra opinión cubierto

en este país que se esté abordando desde el gobierno de españa unas reformas fiscales

revolucionarias pero sí desde la perspectiva de la justicia social y aquí consideremos que no es el momento no nos parece que que sea razonable creemos que aquí también se puede afrontar determinadas modificaciones fiscales en relación con las

en este momento pues nos parece preocupante no sabemos exactamente cuándo se pretende abordar esta cuestión ya le digo que a quienes se les pretende subir la carga impositiva es a quienes en mejor disposición están para pagar y que por tanto

perjudica a la capacidad de recuperación económica porque por lo general a quien irían dirigidas estas modificaciones fiscales es precisamente a quienes

fuera a los mercados financieros es decir que no utilizan sus ahorros para generar inversión productiva

hacer una modificación de la política fiscal en este país para que dentro de unos años si la recuperación económica no ha venido dada por la inversión privada que es básicamente la apuesta que hace su gobierno cómo

herramientas para tener a nuestra disposición mayor capacidad financiera y en relación con el cumplimiento del techo de gasto efectivamente

el techo de gasto y así también lo hemos tenido que hacer por desgracia nosotros y nosotras desde el gobierno de españa pero una cosa es tener que acatar esa decisión y otra cosa es comulgar con ella y nosotros desde luego nunca hemos comulgado con el techo de gasto hemos criticado esa fórmula por lo que suponía

económica y desde su partido es decir usted afirma que desde el gobierno vasco siempre se ha abogado por que

intervenciones por parte de miembros de su partido en relación con la austeridad y con el equilibrio presupuestario la necesidad de equilibrio presupuestario en años anteriores no ahora eh en años anteriores que dejaban mucho que desear en relación con los límites

sí señor soto seguiremos hablando yo nunca he comulgado con el techo de gasto

en los últimos diecisiete años en el parlamento español pero

hemos sido muy críticos he sido personalmente muy crítico pero crítico o no comulgues o no al final

a ustedes les pasa un poco lo mismo en relación al plan covid hemos utilizado cuatrocientos millónes de euros de los cuales trescientos cincuenta millónes han venido de remanentes acumulados no ha sido una reasignación de la reasignación apenas han llegado cincuenta millónes de euros en relación al tema

la reforma fiscal habrá que hacerla que no es el momento porque en este momento cualquier subida de impuestos va en contra del impulso a la actividad económica y la generación de empleo con lo cual no va por buen camino y evidentemente

esta crisis no solo se puede pagar con deuda no solo la pueden pagar

de qué parte de esta crisis tenemos nosotros que asumir desde luego con la subida del dos por ciento del irpf a los que ganan más de trescientos mil euros que es lo que ustedes han hecho en españa

que no sé si políticamente les ha parecido oportuno pero nosotros creemos que hay que hacer las reformas más en serio y en profundidad después hacer una revisión digamos clara en relación a ese asunto no yo creo que de esto tendremos que hablar y hablaremos todo

el gobierno va a seguir manteniendo de todas formas una actitud que combina la expansión razonable en materia presupuestaria con una visión cautelosa y prudente en lo relativo a las cuentas públicas señor soto

en el dos mil veintiuno y una deuda que alcanzará hasta los dieciséis coma nueve por ciento

creemos que es una deuda suficiente para hacer un presupuesto expansivo que permita afrontar la realidad de lo que necesita euskadi

debidamente a la situación económica y a la situación de la pandemia

para garantizar una recuperación económica sostenible la unión europea ha establecido como sabe unas prioridades comunes y que se concretan en una transformación ecológica

se dice que el estado obtendrá hasta ciento cuarenta mil millónes de euros a la vista de las transferencias que recibirá a través de esta iniciativa los recursos procedentes de europa

esta legislatura pero de momento desconocemos la cuantía

y cuánto no sabemos cuando vengan los utilizaremos debidamente hay que continuar con el esfuerzo de recuperación iniciado en los últimos años a través de la inversión pública habida cuenta de sus efectos multiplicadores de su impacto en la productividad y el de servicios públicos ya que una de las primeras consecuencias de la pandemia ocasionada por la covid diecinueve ha sido la revalorización de lo público desde esta perspectiva en las bases compartidas para la reconstrucción social y económica de euskadi desde la defensa de los servicios públicos y las políticas sociales

que se recoge en el acuerdo de gobierno para esta legislatura se afronta esta crisis como una oportunidad para salir de ella con una sociedad más cohesionada con un estado de bienestar fortalecido

estas premisas compartidas alineadas con la agenda dos mil treinta de naciones unidas señalan el camino del gobierno vasco para esta legislatura cuya trayectoria por otra parte ya ha estado marcada por la estrategia de desarrollo humano sostenible su continuidad exige redoblar esta apuesta por un crecimiento inclusivo

y que tenga presente que el crecimiento por si solo no implica bienestar

de manera que fluya bajo criterios de justicia social y medioambiental

de política pública primero recursos propios a través de las aportaciones de las diputaciones

y tercero fondos europeos siempre considerándolos como adicionales a los nuestros porque este país es muy capaz de funcionar con los recursos propios el gobierno vasco tendrá

lista una propuesta solvente y tractora para euskadi

debidamente a esos fondos que no le quepa ninguna duda estamos trabajando en ello de forma transversal

y todas hacen falta alianzas profundas y esfuerzo conjunto espero que el suyo

urriaren seian beste iragarpen handi bat egin zenuten hemen txiki txiki agertzen da la boca del metro no estará dentro del edificio sino junto a reparadoras

gracias señora presidenta señor fernandez de betoño

dos y seis de este mes y creo que expliqué

las razones por las que nuestro departamento y la sociedad pública euskal trenbide sarea consideramos que es necesario proceder a rescindir el contrato de las obras del tramo miraconcha easo de la variante metropolitana

y las causas téncnicas que han provocado esta decisión básicamente la detección de problemas de estabilidad geológica en dos puntos muy concretos

entre ambas estaciones ustedes hablan de

como nos hemos encontrado en el noventa por ciento del trazado y también aquí esperábamos encontrar roca hemos encontrado

de una calidad que impide la excavación que estaba prevista hemos encontrado también de forma imprevista una incidencia que va a suponer un sobrecoste importante

y que requiere aplicar soluciones constructivas no previstas en el proyecto originalmente contratado

realizar un proyecto reformado que recoja las nuevas soluciones necesarias y sacarlo a licitación le anticipé también que nuestro propósito

con la idea de que la o las empresas adjudicatarias estén en el tajo antes del verano a ser posible a finales de mayo y los retrasos en la terminación de la obra sean los mínimos posibles porque nuestro compromiso

es minimizar las molestias causadas a las personas que viven o trabajan en la zona

yo comenté que se ha contado con la información técnica de ciento quince sondeos en toda la zona de la pasante soterrada treinta y cinco sondeos recopilados de proyectos consultivos del entorno efectivamente hay proyectos que se han utilizado

y ochenta específicos que hizo el departamento además de cincuenta perfiles de geofísica en el tramo en concreto que nos ocupa los cuatrocientos cuatrocientos cincuenta metros lineales de túnel pendiente de excavar que son el diez coma siete por ciento de la pasante soterrada

y veintiuno son específicos realizados por este departamento

en ese tramo en concreto el ratio habitual en un proyecto de túnel urbano es de un sondeo cada cien metros

que aquí se han realizado siete veces más teniendo en cuenta el conjunto de los sondeos a tener en cuenta o cuatro veces más si se tienen en cuenta los sondeos específicos realizados para este proyecto mención aparte y suplementaria a los estudios de geofísica pues bien

se ha avanzado en la redacción técnica del proyecto reformado y de cara a la rescisión del contrato se ha encargado un informe jurídico que sirva como soporte a los pasos que se están dando y ets también está hablando con la última adjudicataria

y acordar las labores de trabajo en superficie y de mantenimiento y seguridad que seguirá llevando a cabo en el tramo hasta la nueva adjudicación

igualmente estamos manteniendo contactos informativos con los vecinos comerciantes y hosteleros de la zona urbana afectada por las obras

y atender sus requerimientos con el fin de minimizar las molestias queremos que los trabajos que se desarrollan en superficie continúen con normalidad

para limitar su impacto en la vida de la ciudad la intención de nuestro departamento

que sabe usted que ocurren en ocasiones en obras públicas de cierta complejidad procurando que la solución sea la más adecuada tenga el mínimo coste económico añadido y no alargue demasiado el plazo de ejecución previsto inicialmente ya me supongo que el motivo de la interpelación

sino tratar de impugnar y desacreditar el proyecto en su totalidad es lo que vienen haciendo ustedes desde el primer momento en otras palabras que

y seguir alimentando así la campaña de su formación contra este proyecto

pero mire la variante subterránea del topo de donostia san sebastián no es un capricho como se podría desprender de las afirmaciones de eh bildu no se hace para que se utilice para ir a la playa de la concha no seamos tan ilusos

moderna y eficiente no solo a donostialdea sino a gran parte de la población de gipuzkoa

este oeste que atienden euskotren y el topo

a diferencia de otras áreas metropolitanas donde se ha venido haciendo una importante apuesta

en donostialdea y por sus circunstancias particulares el transporte público no ha sido capaz de absorber el incremento de la movilidad en los últimos tiempos la consecuencia es que el vehículo privado tiene actualmente un peso abrumador del sesenta y seis por ciento de los desplazamientos mientras que el bus supone un veintisiete por ciento y el tren un siete por ciento

que se buscara una solución de pasante ferroviaria por el centro de la ciudad

y permitiera una mejora sustancial de la seguridad en la circulación y en las frecuencias de los trayectos

a una población mucho más amplia y esto se consigue en el proyecto situando las tres estaciones en las zonas más densamente pobladas de la capital

así la estación de bentaberri daba servicio a la zona universitaria y el antiguo

y la de easo atenderá a la población de las zonas de amara

las que viven a menos de diez minutos andando de estas tres estaciones pero es que como he señalado la variante ferroviaria del topo no es únicamente una infraestructura para la capital sino una solución de futuro para mejorar la movilidad de los habitantes de la densa franja que va desde hendaia

calcularon un total de veintitrés coma cinco millónes de viajes anuales

y no parece que esta estimación haya decrecido en los últimos años al contrario si se tiene en cuenta exclusivamente la demanda de la pasante ferroviaria

la previsión es de nueve coma nueve millónes de viajeros anuales en consecuencia me podrá decir

o que prefiere otra alternativa y la verdad es que ya han transcurrido bastantes años desde que se puso encima de la mesa esta alternativa

pero tiene difícil de sostener que es una obra innecesaria

y le podría añadir más desde el punto de vista social económico o de la movilidad descarbonizada no le parece positivo a usted que todas las personas que viven en la franja desde hendaia a zumaia

al uso de su vehículo privado para desplazarse a donostia san sebastián

u ocio no le parece interesante que este sistema de metro permita replantearse la organización de los espacios de superficie en la ciudad

o los ciclistas o que permita

que ocupan actualmente la estación de amara y la playa de vías de acceso en cuanto a la rentabilidad social y económica del proyecto
tendremos creo que ocasiones para seguir debatiendo eskerrik asko arriola jauna

señor fernandez de betoño yo he dicho en mi primera intervención lo que he dicho y constará en acta cuando algún proyecto o iniciativa no les gusta especialista en proponer que el monto de la inversión asignada se destine a gastos sociales o a otras necesidades que ustedes consideran más acuciantes

esa autovía que la gente de euskal herria bildu no utiliza en sus desplazamientos a narra

de carretera de los pueblos y ciudades de euskadi esas variantes que los de eh bildu no utilizan tampoco y no circulan por ellas o la y ferroviaría

tampoco usarán ustedes ahora para cuestionar

si no existiera la pandemia serían otros los motivos como de hecho así ha sido hasta ahora

forzado se puede y se debe reforzar el gasto social sobre todo en un momento como este y al mismo tiempo se puede y se debe seguir invirtiendo en proyectos de futuro como lo va a hacer el gobierno de españa como lo vamos a hacer nosotros en los presupuestos de euskadi para el próximo año o como nos propone la unión europea

y de lucha contra el cambio climático por cierto la variante ferroviaria del topo encaja perfectamente en los objetivos de movilidad sostenible apuesta por el transporte público descarbonización modernización digital y humanización de la ciudad marcados por la unión europea

dos mil treinta no sé si su grupo suscribe realmente estos objetivos porque

pero luego se opone a todas y cada una de las iniciativas en materia de energías renovables y limpias que se plantean en euskadi en cualquier caso están en su derecho de rechazar un proyecto si no les gusta pero lo que sí le pediría a bildu como lo he dicho en alguna otra ocasión es un poco de coherencia

y que esas mismas razones no valgan para otro proyecto que sí me gusta y que sigue en lo que respecta a otros

le voy a decir otra vez lo que ocurrió en la paralización de la rescisión del contrato

también ha propósito problemas geológicos y con sobrecostos millónarios lo que me llama mucho la atención es que su grupo

y en cambio defiendan ardorosamente la construcción de la futura línea cinco del metro de bilbao que sí está en el programa de gobierno por supuesto

y también ahora ustedes basan su posición su oposición a la variante ferroviaria del topo en que supuestamente esta inversión no tiene rentabilidad social

inversión estimada doscientos cinco millónes de euros número de viajeros estimados nueve coma nueve millónes anuales inversión pasajero año

veinte coma setenta y uno euros línea cinco del metro de bilbao usánsolo inversión estimada cuatrocientos millónes de euros

inversión viajero año sesenta y nueve coma veinte euros las cifras hablan por sí solas esta solución ferroviaria que defienden

supone el doble de inversión tres millónes menos de viajeros y un coste por viajero año que triplica

y antisocial pues tendrán que explicármelo

de un medio de transporte moderno eficiente y sostenible a propósito cuando el metro de donostialdea se culmine y entre en servicio

buenos días muchas gracias presidenta también en este momento voy a hacer una pregunta al señor consejero de transportes iñaki arriola esta vez con respecto al sobrecoste

que se va a incrementar como mínimo entre un cincuenta y un setenta por ciento qué valoración

gracias señora presidenta señora larrea creo que no es la primera vez

que cuando se trata de cuestiones que son de mi competencia directa que afectan a mi departamento mi función no es la de

la de abordar los problemas y proponer soluciones y eso es lo que estamos haciendo con las incidencias surgidas en la excavación del túnel del tramo

gracias mire yo me voy a remontar en este momento a los godos si hace falta si es necesario entender por qué estamos hoy aquí hablando de este asunto en el año ochenta y nueve el departamento de transportes y obras públicas del gobierno vasco presentó el estudio del ferrocarril san sebastián hendaya en el caso urbano de san sebastián tengo el documento el trazado no es exactamente el que ahora se está realizando pero

también se presentó el mismo estudio para bilbao hoy treinta de octubre de dos mil veinte bilbao tiene cinco líneas de metro

vale pero están en sus proyectos vale guipúzcoa solo tiene una

pero no solo eso sino que han tenido treinta y uno años para tomar muestras para realizar un proyecto para pensárselo muy bien para realizar las obras necesarias para conectar zumaia zarauz donostia

infraestructura necesaria que nuestro partido lleva defendiendo desde su presentación aquel año ochenta y nueve

el mar haciendo un túnel tampoco pero es que además

es una de las calles que soportan más habitantes por metro cuadrado en guipúzcoa y me dirán y lo entiendo que a grandes obras grandes contratiempos pero por favor

para evitar derrumbes hacer las catas necesarias y la paralización de la obra justifica la rescisión

que ahora sí tenga en cuenta la ubicación y las circunstancias de hacer un túnel bajo el casco urbano de los más poblados

pero hombre no me diga que no es llamativo semejante incremento usted habló de unos veinte millónes de euros en prensa

y a esto le añadimos dos años más de la previsión de finalización de las obras

le digo que estaremos vigilantes no lo dude señor arriola gracias eskerrik asko larrea andrea arriola jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta señora larrea me alegro

de acometer la ejecución de esta infraestructura que supone sin duda una mejora sustancial del servicio de transporte público para una parte muy importante de gipuzkoa

en este tramo y a preguntas de los medios de comunicación hice una estimación sobre el encarecimiento de la obra a que se refiere su pregunta y cuál va a ser exactamente bueno eso se verá cuando se disponga del proyecto reformado en el que se está trabajando por parte de euskaltrenbide sarea

necesarias para resolver los problemas geológicos encontrados en dos puntos muy concretos del túnel que une

easo y la concha centro esperemos que lo tengamos

antes de final de año en cualquier caso

que se registran en muchos proyectos de esta entidad hay que aclarar cuál es el punto de partida

le diré que el presupuesto de licitación del tramo miraconcha easo es decir el coste que estimaron los técnicos de ets a la hora de licitar la obra

el proyecto se adjudicó en diciembre el diecisiete por cincuenta y tres coma dos millónes de euros con una bajada del veinticinco por ciento sin embargo tanto en marzo de dos mil diecinueve como en julio de dos mil veinte hubo que realizar sendos modificados por un importe de diez coma cinco millónes de euros para abordar cambios en la galería de ataque

de easo asimismo se han aprobado dos actuaciones de emergencia con un coste de algo más de siete millónes de euros la primera en diciembre del pasado año para afrontar

en junio de este año para consolidar las inyecciones de mortero en unas discontinuidades de roca junto a la concha que cruzaron el socavón de la calle zubieta

no son suficientes para resolver en su totalidad los problemas detectados y para conseguir el objetivo de garantizar la plena ejecución de la obra en condiciones de seguridad por eso nada más hacernos cargo del área de transportes coincidimos los técnicos de

tal y como establece la ley de contratos del sector público

y sacar a concurso un proyecto reformado un proyecto que incorporará las soluciones de ingeniería que sean necesarias para resolver los problemas geológicos detectados cuál puede ser el sobrecoste final en este tramo pues no me es posible precisarlo ahora señoría habrá que esperar

y a la nueva adjudicación lo que sí puedo decirle

los costes comprometidos ascienden ya a setenta coma ocho millónes de euros que coinciden casi exactamente con el presupuesto que licitó

ayer hablábamos de política de vivienda hoy también y bueno hablamos también de la herencia de algunas malas decisiones que se tomaron

esta es otra pero también la pérdida de la calificación permanente etcétera cosas que se han ido corrigiendo pero que arrastramos en estos momentos estamos hablando de la promoción de bentaberri y de otras que son promociones de vivienda social en suelo público con unas condiciones de alquiler social pero que al final han acabado en manos de unas empresas privadas que lo único que están buscando

social en el caso de bentaberri son quinientos veinte viviendas que en dos mil veintiocho pierden su calificación de alquiler social y el problema como decía es que estas viviendas están en manos de la ute bentaberri y de testa y detrás de ellas está braxton y detrás de braxton está el banco de lehman brothers que todos y todas recordaremos

renovaciones de contratos de un año cuando en la mayoría de los casos deberían de ser de tres años una situación que ponen en indefensión a los inquilinos apuran hasta el límite también el límite de ingresos

que pretenden hacer con el alquiler en dos mil veintiocho han tenido en riesgo de desahucio a victoria una

y no pudo pagar el alquiler por primera vez y el fondo automáticamente le interpuso una demanda de desahucio afortunadamente gracias a la presión de estos desahucios de alokairu y de mucha

la deuda pero seguimos viendo empresas que hacen negocio y que negocian con el derecho a la vivienda pues apurando la paciencia y la tensión de la gente no contentos con esto hace unos días enviaron

se les alargó seis meses el contrato en virtud del real decreto ocho barra veinte el artículo veintidós el estado de alarma

luego algunos y algunas vecinas llamaron por teléfono a la empresa y les dijeron que se trataba de un error pero ese error no se ha visto reflejado en ningún documento

empresas piratas bentaberri no es el único caso que tenemos

buitre el ayuntamiento de donostia en dos mil diecinueve aprobó también esta moción además por unanimidad de todos los grupos en la que solicitaba al gobierno vasco que elaborase acordase implementase

los casos de indefensión en bentaberri entonces nuestra pregunta y nuestra petición vuelve a ser otra propuesta productiva y constructiva hacia el gobierno va a ser si el gobierno vasco va a crear o se va a sentar también con la empresa a negociar

de las familias que en estos momentos están en bentaberri y va a garantizar por tanto la función social de la vivienda tanto ahora como en el año dos mil veintiocho que va a perder la calificación permanente esa es nuestra pregunta esa es nuestra petición

viviendas pero también para otras viviendas de euskadi que están en similares características creemos que el gobierno tiene la capacidad de hablarle de tu a tu

en la indefensión ni ahora ni en dos mil veintiocho cuando se acabe la función o el alquiler social eskerrik asko eskerrik asko martínez jauna

fue la primera promoción de vivienda protegida para el alquiler en un momento en que toda la vpo

y las viviendas se podían descalificar a los veinte años la llevó a cabo una ute privada

por un plazo de setenta y cinco años con la obligación de mantener la vivienda en alquiler doce años y con una calificación de vpo por treinta años la segunda singularidad es que los inquilinos de bentaberri desde su primera ocupación

están en el rango alto de las rentas protegidas pagan a día de hoy un alquiler entre seiscientos cincuenta y novecientos sesenta euros mensuales

teniendo en cuenta la zona donde está y los precios de donostia san sebastián

amplia lista de espera de inquilinos pero estas cantidades triplican la renta media del parque de alquiler del gobierno

parque al que nos dedicamos preferentemente yo entiendo la preocupación de futuro que puedan tener las personas que residen en estas viviendas

mientras se cumplan los requisitos acordados como le he dicho

después por intervención del gobierno en dos mil diez y dos mil diecinueve

hasta el dos mil veintiocho es verdad que concluido este plazo la empresa podría bien revisar los alquileres libremente o bien proceder a la venta

que en dos mil setenta y tres todas estas viviendas y el suelo en el que se levantan

por setenta y cinco años mientras tanto nuestro departamento va a seguir visando los contratos nuevos que se realicen en esta promoción para asegurar que tanto la empresa como los inquilinos cumplen las condiciones de acceso a la vpo

estamos a más de siete años de la fecha que termina la calificación de viviendas de vpo de bentaberri y por lo tanto hoy no podemos anticipar qué va a suceder

de vpo podría de hecho lo ha hecho en dos ocasiones

sí podríamos si antes de dos mil veintiocho se produjera un cambio de propiedad en la promoción

se pretenden vender en bloque en este caso tendríamos que revisar los ingresos de cada uno de los inquilinos y quien superase los treinta y nueve mil euros anuales tendría que salir de bentaberri

la cuestión es otra teniendo en cuenta las necesidades de vivienda que se concentran en los colectivos más vulnerables

porque esta cantidad es más de un tercio de todo el presupuesto anual de vivienda

no aumentaríamos la oferta de vivienda

teníamos que dejar otras muchas que hacer otras muchas cosas

que en el dos mil setenta y tres estas viviendas pasarían a ser propiedad
del gobierno porque acabaría el derecho de superficie muchas gracias eskerrik asko

los plazos de alquiler dos veces eskerrik asko arriola jauna

legebiltzarreko presidente andrea legebiltzarkideok egun on en primer lugar quiero aprovechar esta oportunidad para trasladar

prestar a los miles y miles de profesionales que trabajan en nuestro sistema de salud y que de nuevo han de hacer frente a las consecuencias de esta segunda ola covid hemeretzi muy especialmente

tratando además de mantener el resto de la actividad asistencial con normalidad volvemos a sufrir tensiones en la atención primaria y en la hospitalaria

la disposición de medios materiales y demás profesionales nos ayudarán a hacer frente con más garantías a esta segunda ola es por ello que aprovecho también la ocasión

a las personas que desde sus ventanas y balcones aplaudían a nuestro personal sanitario que vuelvan a brindarles su apoyo en esta ocasión

primaria señora ubera colapso paralización o disminución importante del ritmo de una actividad destrucción o ruina de un sistema

nada más lejos de la realidad aquí lo que estamos gestionando es una realidad muy difícil derivada de la irrupción de la covid en nuestras vidas porque eso es lo que ha hecho irrumpir en nuestras vidas

aunque hay quien crea que nada ha cambiado y todo hay que observarlo desde el mismo prisma cada día acuden a nuestra red de atención primaria entre diez mil y quince mil personas a hacerse pruebas de pcr

en una semana por ejemplo la de diecinueve de octubre se atendieron presencialmente a más de ciento treinta mil personas y el doble por medios telemáticos

que hablen de colapso hablan de la fortaleza de un sistema que hizo un esfuerzo extraordinario a partir del mes de marzo y que deberá volver a hacerlo si no logramos revertir la curva de contagios en breve ese esfuerzo deja daños claro que sí obliga a esfuerzos adicionales a priorizar a retrasar otras actuaciones cansa a las personas pero nada parecido al colapso y en este tiempo

tanto las de medicina como las de enfermería con sus pacientes como las interconsultas entre profesionales de atención primaria y hospitalaria a este respecto

hacia la recuperación de la atención presencial pero me temo que en esta nueva situación de limitación de movimientos ante el temor de las personas usuarias y la necesidad de protección de los y las profesionales este proceso se resienta la crisis de la covid

entre los profesionales de atención primaria y hospitalaria y este es un valor que no debe perderse una vez superada la crisis y esta medida

de aumento de plantillas y de actuaciones de formación otra novedad que ha llegado para quedarse es la creación de un stock estratégico

les recuerdo que hemos invertido más de ochenta millónes de euros en la adquisición de material sanitario para los y las profesionales

nuestra apuesta por la atención primaria es permanente de hecho dentro del plan de actuaciones del departamento de salud que se plasmará en un documento marco estratégico

en diferentes ámbitos y que la dotarán de un espacio propio las medidas relativas al personal implantación de nuevas

pero ya en junio se implantaron veintitrés plazas de auxiliares administrativas cinco plazas de farmacéuticas de atención primaria y cuatro de fisioterapeutas

de vigilancia en diagnóstico y seguimiento gripe en relación a la red de vigilancia se está reforzando con más efectivos y equipos de rastreo

par de semanas que eran cerca de seiscientos personas pues bien

más de seiscientos personas las medidas relativas a inversiones y equipamiento contratación temporal de módulos que faciliten la sectorización de los centros

adquisición y renovación de material y equipos para mejorar la capacidad diagnóstica y la rehabilitación y ampliación de espacios y nuevas consultas en los centros de salud que faciliten la sectorización y el despliegue de nuevas pruebas de diagnóstico de covid no diga señora ubera

las medidas organizativas para implantar en los centros de salud que conllevan a una mayor apertura de las consultas presenciales garantizando la seguridad de los pacientes despliegue progresivo de la consulta telemática puesta en marcha de un plan para reducir la burocracia en las consultas médicas estableciendo colaboraciones

impulsando de nuevo la indicación uso y dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y otros productos sanitarios

conforme al real decreto novecientos cincuenta y cuatro barra dos mil quince de veintitrés de octubre en eso

estando y seguiremos mejorando señora ubera pero no podemos decir que no hacemos nada eskerrik asko

fortaleza la de nuestros trabajadores de osakidetza la de ellos no del sistema no del sistema

ha mencionado usted señora ubera la estrategia para reforzar la atención primaria sé que la conoce sé que la conoce porque se presentó en este parlamento en junio del dos mil diecinueve y usted sabe que se está impulsando y poniendo en marcha con medidas concretas los números que le he mencionado son de junio quiere decir que sean los únicos en las contrataciones que se han realizado

de anunciar que hay nuevas medidas nuevas plazas

en equipamientos e infraestructuras sanitarias que hay nuevas medidas organizativas

hechos y pasos adelante concretos

creemos firmemente en la atención primaria y creemos también firmemente en su fortaleza

respuesta no parece al menos a mí no me parece muy prudente intentar crear una falsa alarma en la sociedad

señora ubera una falsa alarma ahora es la ayuda de todos y todas la que es necesaria

señora consejera no sé si compartirá conmigo que la crisis del coronavirus ha supuesto una situación sin precedentes entiendo que sí

nosotros pensamos que ante la convocatoria de huelga general que se está desarrollando en la sanidad pública vasca estos días

de que el gobierno vasco dé respuesta a las reivindicaciones de los sindicatos de la sanidad pública porque pensamos que lo que está en juego no son sus condiciones laborales en sentido estricto

sanidad pública y de manera urgente además lo que está juego es la capacidad de nuestra sanidad

bien a esta segunda oleada toda la sociedad ha sido consciente en los últimos meses del alto grado de responsabilidad y compromiso ejercido

y creo que nadie afirmaría que si en un momento tan delicado como este estos mismos profesionales

peregrinas por eso pensamos que para entender esta huelga es imprescindible echar una pequeña mirada atrás en el tiempo

ha agravado la situación pero han sido las políticas de los últimos años y el debilitamiento progresivo de nuestro sistema sanitario los que verdaderamente

y los que han provocado que en estos momentos el personal tenga que realizar su labor en condiciones extremas así lo describen ellos al menos son esas políticas en nuestra opinión las que junto a la falta de reacción también del gobierno vasco al no aprovechar la tregua que el virus nos ha dado en verano las que han propiciado

obligados a convocar una huelga en plena segunda oleada por eso sobre alguna de las cuestiones que motivan esta huelga

su opinión sobre la respuesta que ustedes creen conveniente darles falta de inversión en sanidad pública falta de medios humanos reivindicaciones y planteamientos que los sindicatos están poniendo sobre la mesa con motivo de estas huelgas en el año dos mil diez el presupuesto de salud

entre los años dos mil once y dos mil catorce el treinta y tres por ciento entre el dos mil quince y el dieciocho

y algo por ciento verdad que en el dos mil diecinueve algo por encima del treinta y tres por ciento por lo tanto el peso

sistema público sanitario en nuestros presupuestos ha perdido peso de tal manera

de los años que hemos llamado los años de las políticas austericidas

una vez que los principales centros de trabajo ya están construidos y amortizados es lógico que el grueso del gasto vaya al personal que desempeña el trabajo todos los días pensamos que no es ningún mérito especial y sobre todo lo que nos preocupa es que es no dar respuesta a la falta de manos que están reclamando las y los trabajadores

estos días a través de esta huelga nos dicen que somos la comunidad que más gasto sanitario público hace por persona junto a la comunidad navarra

esconde cierta trampa la cuestión no es cuántos miles de euros se gastan es salud pública

del total de la riqueza de la comunidad y en esto no podemos compararnos con el resto de los países de nuestro entorno estamos

la comisión europea en su nueva edición del estudio de la salud en la unión europea el informe que analiza la situación de los sistemas sanitarios señala que el estado español destinó en dos mil diecisiete un ocho coma nueve por ciento de su pib a sanidad mientras que la media de la unión ese mismo año era más elevada nueve coma ocho por ciento pero señalaba también que en euskadi estaba en el cinco coma dos por ciento sobre las altas tasas de temporalidad

relevo generacional hay un desfase muy grande entre la plantilla

trabajando hoy en día hay si no tengo mal los datos

propios planteamientos que han llevado a la huelga a los sindicatos estos días hay cerca de veintiocho mil personas en la plantilla estructural pero de manera habitual hay once mil personas más sin plaza fija trabajando a estas alturas ya

que las plazas que ustedes plantean para el período dos mil veinte dos mil veinticuatro no van a solucionar el problema

anuales los sindicatos reclaman o denuncian que apenas se van a cubrir las vacantes por jubilación

toda una legislatura con la virulencia con la que nos está afectando la actual pandemia también

reivindicaciones de esta huelga se está hablando de la privatización de servicios nosotros sabemos que ustedes no comparten ni tan siquiera la expresión privatización de servicios en la actual osakidetza nosotros sí

de los sindicatos los sindicatos resaltan que la sobrecarga de trabajo la falta de medios la eventualidad la parcialidad en la contratación y la falta de medidas de seguridad son un problema estructural del sistema sanitario que tenemos en estos momentos

de manos privadas como es el caso de la limpieza ambulancias cocinas cafeterías etcétera convertir en objeto de negocio una parte del sistema sanitario para nosotros significa que las empresas que los gestionan están normalmente más preocupadas en optimizar sus beneficios que garantizar un empleo y un servicio seguro que es en lo que sí estaría preocupada osakidetza por eso los sindicatos reivindican

subcontratados y una publificación que garantice el mantenimiento del empleo y las condiciones de trabajo de todo el personal a nosotros esta nos parece una reivindicación

su opinión sobre ella atención primaria me gustaría no extenderme porque no tengo tiempo y porque ya usted en el anterior punto se ha referido a esto la atención

de trabajo una sobrecarga de trabajo que es sistemática y que en este momento de la pandemia está siendo bastante evidente

es la responsable de la actual extenuación del personal que es lo que ellos están diciendo estos días esta situación como decía no se produce solo a consecuencia de la pandemia y desde luego nosotros no queremos minimizar el impacto que la pandemia está teniendo sobre el sistema lo conocemos perfectamente

un año esta reivindicación concreta ya derivó en tres jornadas de huelga convocada por los sindicatos por lo tanto no debe ser tan nueva esta preocupación

y pensamos que tras aquellas huelgas el año pasado

a atajar este problema se dedicó a poner parches asistenciales que lo único que han conseguido es

y en todo caso sino empeorar desde luego no mejorar la calidad asistencial que se ofrece a la población un año más

esta problemática los sindicatos denunciaban que se agravaba con la llegada del periodo estival

este año lógicamente a la ya habitual sobrecarga que sufren las y los profesionales se le añade la carga de trabajo derivada del control y seguimiento del coronavirus tarea que una parte muy importante como ya se ha dicho también está asumiendo

primaria y nosotros queremos saber su opinión sobre estas cuestiones que plantean los sindicatos estos días de movilizaciones porque seguimos viendo a pesar de sus palabras iniciales que sigue faltando la negociación del gobierno de osakidetza con los sindicatos

estos días de huelga en un contexto tan complicado como el actual se tendría que haber potenciado el diálogo se tendrían que cumplir acuerdos alcanzados anteriormente

colectiva por eso queremos conocer qué propone el departamento para dar respuesta a las cuestiones planteadas por los sindicatos estos días nos parece fundamental

resuelvan estas cuestiones y este importante conflicto eskerrik asko

legebiltzarreko presidente andrea por supuesto que comparto señor hernández que estamos en una situación excepcional e impensable mire no

mantenemos con los sindicatos tampoco quiero entrar a valorar las reivindicaciones laborales ni las justificaciones de las movilizaciones

de forma clara y sencilla las iniciativas que el departamento tiene en esta materia

estamos hablando y seguimos hablando lo dije en mi primera intervención como consejera de salud y lo repito hoy aquí en esta cámara

la confrontación en el ámbito de recursos humanos se plantean diferentes actuaciones consolidación y ampliación de la plantilla la realidad nos muestra que contamos con un porcentaje de personal eventual

sino que vienen dando respuesta a necesidades organizativas de carácter permanente y estructural necesidades derivadas

y servicios hay un número no la totalidad pero hay un número actualmente con el fin de contribuir a un mejor dimensionamiento de nuestras estructuras y siendo conscientes de que la necesidad de seguir dando respuesta

se está realizando un estudio sobre la contratación de carácter eventual con el fin de determinar qué porcentaje de eventualidad se ha de consolidar como estructura

requiere de una actualización para dar respuesta a los nuevos modelos organizativos incluso de nuevos perfiles profesionales como por ejemplo en el sector de la investigación o

estabilización oferta pública de empleo actualmente se está

que esperemos que esté terminada para la totalidad de las categorías objeto de convocatoria en marzo del dos mil veintiuno asimismo se va a iniciar el proceso de negociación de distribución de la oferta de tres mil trescientos treinta y cinco plazas correspondientes a las ope de dos mil dieciocho dos mil diecinueve para establecer la distribución

con la programación de las convocatorias y su ejecución junto a ello se analizarán medidas a introducir en los sistemas de gestión de los procesos de las ope que permitan agilizar su resolución movilidad concurso de traslados

establece las bases del procedimiento del concurso de traslados abierta y permanente para la provisión de destinos básicos

el acuerdo quiere dar respuesta a la necesidad de regular unas nuevas bases de los procedimientos voluntarios

en la adjudicación de destinos y que favorezcan en mayor medida a la conciliación de la vida laboral y familiar

se han de buscar fórmulas que permitan mejorar la calidad de la contratación para ello se iniciará en mesa sectorial un proceso de negociación de un nuevo acuerdo de contratación temporal para su implantación y puesta en marcha

se trata de adecuar ciertos aspectos de las listas de contratación temporal a fin de mejorar con una mayor eficacia eficiencia agilidad

asimismo se iniciará un análisis para presentar una propuesta de criterios que identifiquen las plazas de difícil cobertura y medidas que puedan promover su cobertura

considerando la salud como un elemento transversal promoviendo la cultura de la salud y bienestar de nuestros trabajadores y trabajadoras el contexto actual

ha puesto de relieve la importancia de la prevención de riesgos se ha realizado una potente estrategia de información

en el ámbito de la prevención de la infección covid entre el personal se trata de poner a disposición de todo el personal los conocimientos necesarios para disminuir al mínimo los posibles riesgos derivados de la atención sanitaria es necesario garantizar que las y los profesionales del ámbito sanitario

y con un seguimiento periódico de su estado de salud para ello se establecen distintos protocolos

dos en profesionales de osakidetza o el seguimiento de los y las profesionales con de base o vulnerables reserva estratégica de material siendo conscientes de la necesidad de dotarse de una reserva estratégica de material de cara a la adquisición gestión y distribución de material se han adoptado dos medidas a destacar el establecimiento de un sistema de compra corporativa en centro logístico de distribución la recepción y la distribución de material en definitiva se trata de asegurar la disponibilidad de los equipos de protección individualizada necesarios para garantizar la protección y seguridad de los y las trabajadoras

en el ámbito de la comisión corporativa de seguridad y salud laboral durante el año dos mil diecinueve se continuó con el abordaje de la evaluación del

con el objetivo de aprobar el protocolo de evaluación de factores psicosociales esta evaluación del área psicosocial persigue los mismos objetivos

pretende identificar y evaluar los factores psicosociales de riesgo presentes en una situación de trabajo para eliminarlo

estableciendo las medidas preventivas que resulten oportunas apoyo emocional a los

el objetivo principal del programa de actuación consiste en dar una respuesta

y de los centros y servicios dependientes de las tres redes

apoyar e intentar minimizar el impacto emocional en grupos afectados por la infección por coronavirus conciliación

facilitar la conciliación corresponsable de la plantilla entre las acciones a trabajar y desarrollar realizar un análisis de las medidas de conciliación existentes en osakidetza y de su disfrute proporcionado y mujeres analizar la posible implantación de medidas de flexibilidad horaria para evitar

realizar un estudio de mejores prácticas de conciliación en organizaciones con problemáticas equiparables

de medidas y un conjunto de ámbitos que tenemos planificados eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea hernández jauna zurea da hitza

señora consejera por su respuesta a mi interpelación aunque

con medidas que si no entiendo mal son básicamente las que vienen ya recogidas en el programa vamos a tener el lunes ocasión en la comisión de salud de este parlamento de

sobre su planificación la planificación del departamento para esta legislatura más allá de entrar a valorar sobre lo que nos parece bien mal o regular

creo que no me responde de manera explícita a lo que realmente es mi interpelación porque yo le preguntaba

cómo van a dar ustedes respuesta a los planteamientos que los sindicatos han puesto sobre la mesa con esta huelga a no ser que he

que la respuesta que ustedes consideran adecuada a los planteamientos que están haciendo los sindicatos estos días es simplemente el programa de gobierno

entiendo antes de sustanciar esta huelga

en araba ya conocían porque ya es público el acuerdo de gobierno y muchas de esas medidas que usted está planteando y que además

usted habrá podido trasladarles de manera directa

como le digo nos preocupa que en esta segunda oleada tengamos a nuestros profesionales de la sanidad pública en una huelga y porque no creemos

que todos compartimos que han demostrado su gran responsabilidad esté secundado una huelga como le decía anteriormente por razones peregrinas y yo estoy seguro que usted tampoco lo considera

y por lo tanto hay que dar algún tipo de respuesta concreta a los planteamientos concretos que ellos están haciendo desde luego

y pensamos que si ante una serie de medidas que ellos ya conocían

del gobierno esa huelga sigue en vigor estos días si no después de escucharle a usted hoy pues desconvocarían las dos próximas jornadas de huelga que tienen

esos planteamientos esa huelga sigue en marcha es que no están dando ustedes una respuesta adecuada desde luego al menos para resolver el conflicto

motivado por planteamientos serios y que nosotros compartimos por parte de los sindicatos y por eso pedimos a mí no me gusta exigir al gobierno es una expresión que suelo usar muy poco

sobre las medidas concretas que los sindicatos están planteando en relación

profundamente seguramente ese acuerdo no gustará del todo a los sindicatos

y a otros menos y seguramente también les hará

de alguna manera sus políticas y los planteamientos que usted me ha explicado en su intervención pero desde luego estamos convencidos de que si eso pasa

si la respuesta es que ya tenemos ese programa de gobierno y que esta es la respuesta que damos

pues lo vemos complicado nosotros le pedimos que conviertan la sanidad pública en una prioridad eso es fácil decirlo eso seguramente lo podemos decir todos

humanos y materiales suficientes es imprescindible para el bienestar colectivo pensamos que el mejor homenaje seguramente ya lo dicho en alguna ocasión y me ha oído usted decirlo a las y los profesionales por parte de la sociedad vasca después de los aplausos que les dimos

las normas de prevención pero también pensamos que el mejor homenaje que puede y debe hacerles el gobierno vasco es escucharles negociar con ellos y las respuestas concretas a sus demandas

movilizaciones lo que yo le trasladado es cuáles son las iniciativas y medidas

porque para este gobierno la sanidad pública ya es una prioridad

en personas y en materiales en el conjunto del departamento de salud es constante y lo va a seguir siendo en concreto

que viven en euskadi las veinticuatro horas al día los trescientos sesenta y cinco días del año en la que llegamos a tener trabajando

personas con alta cualificación profesional con un conocimiento que deben actualizar constantemente por los avances de la ciencia y con unas nuevas tecnologías emergentes que tenemos que integrar con éxito en nuestra organización eso solo tiene

que es mejorar la atención que estamos prestando a la población vasca y siempre desde unos profesionales excelentes y con unos profesionales excelentes ahora nos enfrentamos a unos retos tales como la concentración democrática el envejecimiento poblacional la gestión de la cronicidad

contexto en el que además los avances tecnológicos exigen una actualización continuada eso es lo que pretendemos lo que ofrecemos

adaptando su modelo de organización en estos momentos se está haciendo

la coordinación entre profesionales por tanto la atención que damos a los y las pacientes somos conscientes de que ello no es posible sin la implicación y el profesionalismo de las personas que trabajan en osakidetza

yo ya he mantenido una primera reunión con todos los sindicatos con representación en la mesa de negociación

creo sinceramente que la solución es posible y que para ello ambas partes tenemos que demostrar nuestra voluntad de entendimiento

y nuestra mano siempre va a estar tendida eskerrik asko eskerrik asko sagardui andrea gai zerrendako

de la incidencia del covid en euskadi es claramente preocupante los datos así nos lo corroboran

en esta segunda ola de la pandemia hemos alcanzado cifras récord ayer mismo la cifra de

preocupan especialmente como usted bien sabe consejera los contagios entre los jóvenes que representan el grueso de los positivos que se están dando en estos momentos también en estos instantes hay que señalar

que en los últimos doce días se ha incrementado un cincuenta por ciento

un total del treinta y dos por ciento por lo tanto el estar mejor que otras comunidades autónomas como nos decía esta mañana el señor

de consuelo para nada porque seguramente estemos peor que otras comunidades autónomas y mañana podemos incluso ser la que tengamos la cifra más alta de contagios nos decía también el señor lehendakari esta mañana que hay que tomar

indudablemente tendrá que ser así y nosotros apoyaremos esas medidas siempre y cuando vayan avaladas

técnicos pero precisamente por esa razón señora consejera tenía que haber sido el lehendakari el que compareciera el lunes a la tarde y no usted que nos merece todo el de los respetos

esas medidas comprenderá que en este escenario tan crítico reclamemos la presencia del máximo

responsable del gobierno vasco como está sucediendo en otras comunidades autónomas que las personas que están compareciendo principalmente son los máximos

de que obviamente dé la sensación de que se está escurriendo el bulto o que pues el lehendakari en esta situación quiere pasar un tanto

en estos momentos también desde la coalición partido popular ciudadanos consideramos que es necesario ejercer un ejercicio de total transparencia y trasladar mensajes claros y no mensajes cambiantes y mensajes contradictorios como ha sucedido en relación a los criterios que este gobierno

que los confinamientos no eran de utilidad y que no tenían sentido y el lunes pasado ocho días después se nos señala que los confinamientos tienen sentido

provincial señora consejera y en lo que a su departamento corresponde en este escenario tan complicado en el que están

en el que tenemos una atención primaria saturada servicios telefónicos colapsados los cupos de los médicos también se están incrementando el número de rastreadores

va a adoptar usted como responsable de la sanidad vasca para reforzar la atención sanitaria en un momento tan complicado eskerrik asko

ha quedado constancia de cuáles son las actuaciones que está desarrollando el departamento de salud para fortalecer el sistema sanitario no solo

sino también para fortalecer nuestro sistema de salud para los retos que el futuro que existe tras el covid requiere y ahora

las medidas directas fortalecimiento del personal

organizativos para dotarnos de mayor agilidad disposición de todos los materiales de protección necesarios adecuación de las instalaciones para acoger más enfermos y más y más medidas y ya hemos mencionado

durante todas las intervenciones a las que no van requiriendo y medidas indirectas también aquellas que puedan condicionar la presión sobre el sistema sanitario también las conoce y

la propagación del virus incluyo aquí también

e incluso el esfuerzo en la vacunación de la gripe que estamos haciendo para evitar la confluencia de las dos enfermedades eskerrik asko eskerrik asko

y tan crítico ese liderazgo le corresponde al señor lehendakari criterios cambiantes improvisación y más medidas señora consejera cuando precisamente además somos la comunidad autónoma que más gastamos en sanidad por habitante mil ochocientos uno euros

que es adecuado solicitarles más medidas y un esfuerzo más en este sentido para evitar situaciones complicadas como

yo sigo con la respuesta a la pregunta al margen de las actuaciones adecuadas a los hospitales según el protocolo previsto para poder acoger

tiene que ser no puede ser de otra forma la única respuesta o la misma respuesta

de nuevas plazas tanto de enfermería como de medicina de familia ya hemos comentado que eso ya se inició en junio

seguiremos implementando nuevas plazas estabilización de plantillas y contratación para reforzar asistencialmente las actividades programas necesarios aumento de los equipos de rastreo y ya le he dicho dijimos que eran seiscientos ahora son ya más de seiscientos

continuamente contratación temporal de módulos que faciliten la sectorización de los centros y el control de las colas de pacientes para la realización de pruebas

y ampliación de espacios y nuevas consultas apertura de las consultas presenciales garantizando la seguridad de los pacientes y de los profesionales despliegue progresivo de la consulta telemática puesta en marcha de un plan para reducir la burocracia y las consultas médicas estableciendo colaboraciones con los departamentos de educación

el uso y la dispensación de medicamentos no sujetos a prescripción médica y otros productos sanitarios por parte de la enfermería conforme al real decreto novecientos cuarenta y cinco barra dos mil quince de veintitrés de octubre señora garrido

gracias señora presidenta bien el once de octubre la televisión pública vasca

la guardia civil un estado dentro del estado en el que se trata a este cuerpo de institución corrupta torturadora represora en cataluña entre otros calificativos más recientemente la misma televisión pública la nuestra la de todos ha emitido un programa titulado euskal herria y libertad dirigido por un cineasta francés y cuyos derechos pues habría adquirido también nuestra televisión y que presenta al que fuera jefe la banda terrorista eta josu ternera jose antonio urrutikoetxea como

no es la primera vez que los medios de comunicación públicos emiten programas con el ánimo de atacar las instituciones comunes en un caso o con la intención de blanquear las trayectorias criminales de personas que han pertenecido o que han colaborado con la banda terrorista

señor consejero muchos ejemplos de visiones como poco equidistantes retratos en dos mil diez hablan los ojos dos mil doce

todavía estamos esperando que se empiece a aplicar la ley de víctimas del año dos mil ocho doce años

que es una ley que obliga a la promoción del compromiso de los medios de comunicación particularmente los públicos con

no tengan cabida en los medios de comunicación públicos

lleva por fin incluido el desarrollo de la ley que todavía estamos esperando como digo doce años más tarde además

también hay ejemplos de programas en los que claramente se persigue socavar desprestigiar ya no es solo criticar

y presentarnos una supuesta democracia española de baja calidad

calado ha permeado a otros grupos políticos de esta cámara que otrora en otro tiempo

todo esto comparado por supuesto con el edén que es siempre el gobierno el gobierno dirigido siempre por el partido nacionalista vasco

a ese sistema de corrupción total que impera en españa le puedo poner muchos ejemplos la estrategia de la crispación el virus de la corona españa cada vez más ultra felipe sexto el último rey de españa torturas el crimen mejor escondido los tentáculos de interior

monográficos dedicados a partidos considerados contrarios a la ideología y a la tendencia del gobierno por ejemplo

u operación ciudadanos qué hay detrás todavía no he visto ni un solo reportaje ni uno que critique lo más mínimo al partido nacionalista vasco

pero es que al pnv ni un solo reportaje que lo critique

pues ciertas técnicas mucho más concretas subliminales como

la obsesión por no pronunciar la palabra españa siempre hay que pronunciar la palabra estado lo cual lleva a situaciones que son la verdad kafkianas rocambolescas

de la casa este marcado sesgo ideológico de

responden claramente a una intencionalidad política que es crear un estado de opinión favorable claramente a unos intereses políticos determinados

en un medio privado pero es que ya en un medio público esto ya es intolerable es intolerable todo esto además desde una televisión pública que es una radio televisión pública que es de las más caras que existen en españa de las más caras qué se hace además con mucha parte de este dinero pues esta campaña de desprestigio de las instituciones comunes

un programa político que además pretende excluir a otros

de que siempre se recurre a una serie de productoras de confianza hay alguna que ya la hemos tocado en este parlamento del que fuera además o que en su momento perteneció al que es todavía por cierto director de la etb que ha producido además bastantes de los programas que he citado anteriormente y que de dos mil catorce a dos mil dieciocho pasó de contratar con la radio televisión pública

a tres coma dos millónes de euros la verdad es que es un negocio redondo

hacen negocio y de paso hacen felices a los amiguetes lo cierto es que todo esto se hace con dinero público vuelvo a insistir

pero es que esto es un medio público la propia legislación la propia legislación

hace poco cuando ha habido que nombrar al director de la etb que nos hemos enterado como suele ser habitual por la prensa pues

en este parlamento para tratarla además con urgencia y para intentar sobre todo

han pospuesto la discusión de la proposición no de ley y mientras tanto pues ya se ha nombrado ha sido nombrado el nuevo director de la etb cuando ha tocado sustituirlo y cuando ha habido que nombrar a este director de la etb se ha optado por nombrar a alguien de la casa no de la etb

en cualquier país europeo con el que siempre dicen querer compararse en el gobierno vasco esto ya habría provocado no la dimisión del consejero responsable

este tipo de nombramientos hay que hacerlos por concurso público con asesoramiento de un comité externo y con comparecencias en la comisión de control de la radio televisión pública

hay además temas de personal que hoy no incidiré porque estamos todavía solicitando la información

hay gran cantidad de trabajadores en situación por lo demás bastante precaria que obedece

para qué sirve una televisión pública para qué debe servir mire una televisión pública tiene que servir para proporcionar noticias e información de manera imparcial

tiene que servir para apoyar el aprendizaje de las personas de todas las edades y para contribuir a una formación crítica de una opinión crítica sobre

el pluralismo político económico y social y esto señor consejero la verdad es que está por ver artículo tres

que se ha citado en este parlamento recientemente ya habla de una serie de principios que hay que respetar objetividad veracidad imparcialidad distinción y separación entre opinión e información

de igualdad pluralismo político religioso social cultural defensa promoción de valores cívicos de la convivencia reconocidos en la constitución y el estatuto de autonomía respeto

a la fama de las personas protección de la juventud y la infancia

la verdad es que está todavía por cumplir o como dice retos

pendientes por cumplir es claro que no se cumple la propia ley de la radiotelevisión pública es tal la falta de independencia pero es por todos conocido en este hemiciclo es que

que es que hasta el propio lehendakari esta mañana ya no ha tenido más remedio que reconocer

un mayor equilibrio de voces hasta el propio lehendakari lo ha acabado reconociendo en este contexto señor consejero

resulta esencial conocer qué modelo de televisión pública es el que defiende el gobierno cuál es la finalidad y el beneficio social que se desprende del mantenimiento de una de las televisiones públicas más caras que hay en españa y que solo representa a una parte de la sociedad por todo ello señor consejero le interpelo de la siguiente manera cuáles son los propósitos o la posición de su departamento en torno al claro sesgo ideológico y a la falta de pluralismo que existe en tantos programas

eguerdi on la ley de creación de e i te be solo habla del gobierno vasco en dos ocasiones en primer lugar lo hace en los artículos dieciséis y diecinueve

y luego lo hace y también en los que se fija la responsabilidad del gobierno en ambos procesos y en segundo lugar lo hace en los artículos veintitrés y veinticuatro

las obligaciones de programación derivadas del servicio público que los medios de e i te be deben cumplir

de interés público estimen necesarias todas las demás cuestiones que afectan al grupo de comunicación público vasco las deja en manos de este parlamento del consejo de administración de e i te be de la dirección general y de los profesionales del grupo

usted tiene la libertad de hacer lo que le parezca en esta cámara y de traer por supuesto

cuestiones le parezcan oportunas y no tengo ninguna duda de que lo hará su coalición política en virtud de la representación que obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas de julio la presencia que le corresponde en el consejo de administración de e i te be órgano de gobierno del grupo donde se abordan todas las cuestiones que tienen que ver con su funcionamiento

ustedes tienen el derecho y la representación que les permite participar en la gestión de e i te be así mismo en función de esa misma representación popular

órgano parlamentario donde la ley ha fijado la responsabilidad de hacer el seguimiento y el control del funcionamiento de e i te be y de sus programas

le sugiero que lleve a esa comisión el debate porque creo que es donde deben plantearse sobre las cuestiones que en su opinión afectan al funcionamiento de e i te be el gobierno

y establecerá las obligaciones de programación que e i te be debe cumplir como ha sido hasta ahora en el contrato programa que debería ser renovado en dos mil veintiuno por tanto

los que establece la ley de creación y no nos pida que vayamos más allá y le invito a plantear las iniciativas que usted considere oportunas allá donde debe he sido profesional de e i te be he sido director del medio e i te be

siempre he intentado defender la autonomía de los medios de e i te be

de las personas que desempeñan sus tareas en los ámbitos de la información el entretenimiento la programación

de todo tipo en el grupo e i te be e intento y he intentado

de las personas y los medios de e i te be vinieran estas

o de los grupos de la oposición y no voy a entrar a valorar consideraciones ideológicas editoriales o políticas que ha realizado usted sobre la línea de e i te be

los grupos políticos y sociales hasta el punto de no satisfacer a nadie

ni a los partidos de gobierno ni a los grupos de la oposición creo que así debe ser como sucede con todos los medios de comunicación públicos y privados

defiendo la profesionalidad de los trabajadores y gestores que hacen información y entretenimiento en e i te be sean estos periodistas programadores ingenieros cámaras

que es frecuentemente controlada como debe ser por este parlamento y diariamente evaluada por la ciudadanía razón primera y última del ser

porque esta ciudadanía con sus decisiones diarias con opciones diarias de consumo respalda u obvia las emisiones en televisión

de e i te be como ciudadano me reservo el derecho a la crítica

he sido interpelado sobre una emisión de e i te be titulada

se trata de una obra audiovisual independiente de nacionalidad francesa

audiovisual francés que ha contado con la financiación pública de un buen número de instituciones francesas casi todas ellas públicas

dos exministros del gobierno francés y un buen número de representantes políticos franceses

sobre los contenidos de este documental lo he visto y en resumen diría que recoge los puntos de vista de los responsables de la izquierda abertzale que tras muchos años de connivencia o complicidad

el fin de la violencia en su movimiento muestra también las opiniones de algunos de los representantes internacionales que acompañaron

que participaron en la representación pública del desarme de eta añadiría como opinión personal

de lo sucedido realmente en nuestro país con respecto

y el relato de quienes participan en la película documental

el relato del documental va por un camino y la realidad ha ido por otro y poco más puedo decir sobre este contenido no obstante antes de terminar y desde el respeto a las decisiones de los profesionales de e i te be sí quisiera añadir dos consideraciones

uno no es fácil de entender que la emisión de un documental programada para recordar el final de la utilización de la violencia por parte de eta

se limite a recoger el testimonio de una parte hubiera sido preferible haber tenido la posibilidad de escuchar otras voces y puntos de vista que el documental emitido

y dos me parece también criticable que un documental que recuerda

ilegítima e injusta que eta práctico no recoja la opinión ni el testimonio de ninguna de las víctimas que aquel terrorismo causó eskerrik asko

la última parte en lo que entiendo que además es el reconocimiento de usted como portavoz del gobierno vasco de lo que ha podido suponer la emisión

sobre muchos grupos de personas y particularmente las víctimas y en ese sentido le agradezco su intervención entiendo también la primera parte como responsable usted político y de gestión último de su consejería que ha hecho derivando evidentemente en el consejo de administración

no solo pero sí los grupos parlamentarios de esta cámara y deriva usted ahí el control pero hombre evidentemente los grupos políticos que nombran a personas y que están ahí nosotros también nombramos y nombraremos a un representante pues evidentemente el gobierno se asegura siempre pues una mayoría y sobre todo lo hemos visto en la forma de selección y en la forma de dirección y en la forma sobre todo

de lo que ha sido de lo que son los directores o los gestores de la e i te be yo por eso creo que es importante

yo creo señor consejero que seguramente usted también reconoce conmigo que es que la etb tiene problemas sistémicos de estructura

recurrentes y yo creo que es tiempo de abordarlos creo sinceramente y confío en que seamos capaces de desarrollar una televisión pública

no solo la pluralidad sino también el pluralismo no ha entrado usted en ese debate pero es habitual que cuando se critica la falta del pluralismo en este caso del medio público radio televisión vasca o la e i te be usted saque pues un documento

eso es pluralidad pluralismo es otra cosa pluralismo es reconocer como un valor positivo

fomentarla y sobre todo no establecer un control al final absoluto por parte del grupo político en este caso dominante que hace que poco a poco se vaya creando una corriente de opinión

más o menos permanente y sobre todo más o menos influyente también en el resto de los medios porque no hay que olvidar

tiene muchos medios a su favor el control de los medios de comunicación pública por parte de los gobiernos es algo muy recurrente en todas las democracias avanzadas y es algo que se discute mucho y yo sinceramente creo que es posible deseo

yo sí creo que es posible tener un medio de comunicación público realmente independiente y sobre todo realmente imparcial que se dedique a los tres principios que le he dicho antes los tres principios que le he dicho antes que la propia ley de la etb los desarrolla son los principios de funcionamiento por ejemplo de la bbc

porque lo contrario es tener otro medio más que acaba siendo controlado por un partido por un poder político determinado que lo que hace es simplemente además es competir por cierto con una cierta competencia desleal con los medios de comunicación privados que usted también conoce porque también ha sido director de un medio de comunicación privado y por lo tanto sabe perfectamente de lo que estamos hablando me dice que con un criterio

persona además de la máxima confianza no me diga que el director que han designado no es de su máxima confianza personal política etcétera hombre

yo creo que eso es algo que lo vemos absolutamente todos los grupos de esta cámara incluso ustedes mismos no es que tiene un perfil gestor pero bueno qué es un perfil gestor no que gestiona que gestiona bien pero bueno

es otra cosa por eso es tan importante quién es el director

una enmienda a la propuesta que se ha presentado que ha presentado otro grupo político relativa al proceso de selección del director de la etb que es tan importante

una cierta autocrítica en ellas pero sobre todo lo que es necesario es corregir esta situación

desde el escaño señor consejero el pasado día veinticuatro de octubre usted declaro en el diario vasco que la cultura no debía tener una respuesta especial ante la crisis he de decir que fue un titular que me extraño mucho pues desde infinidad de administraciones del mundo incluida esta se ha operado justo en sentido contrario

está afectando muy gravemente a la vida cultural de nuestras comunidades los espacios culturales están sufriendo de manera especial la pandemia algunos de ellos siguen cerrados y los que han abierto tienen que hacerlo con medidas especiales para poder desarrollar su actividad los trabajadores del sector cultural y que a menudo se encuentran en una situación ya precaria se están quedando durante meses sin ningún tipo de ingreso

la vida cultural de la comunidad se ve muy perjudicada por la covid diecinueve al igual que el bienestar y la calidad de nuestra democracia

por qué cree que la cultura no ha de recibir esa respuesta especial ante la crisis zupiria jauna

no me ha hecho la pregunta que me había anunciado no sé a cuál debo responder si a la anunciada o a la que me ha hecho usted aquí voy a intentar

esta crisis sanitaria que comenzó en marzo se va alargar en el tiempo y que sus consecuencias se van a dejar notar todavía por bastantes semanas

por eso creo que va a ser necesario tomar más medidas de apoyo y estamos en relación con los representantes de las diferentes asociaciones e instituciones del ámbito cultural para analizar qué otras medidas se pueden adoptar las consecuencias de la crisis en el mundo de la cultura están siendo diferentes

respuestas diferenciadas habría que diferenciar en primer lugar entre el sector público y el privado el parón de la actividad o el descenso

pero las consecuencias no son comparables en el ámbito público el descenso de actividad ha obligado a reducir los gastos de funcionamiento y ha dejado en suspenso muchas de las actividades previstas en museos teatros auditorios

esta crisis va a obligar a las administraciones públicas a igualar el desfase que se producirá entre los ingresos y los gastos en algunas instituciones culturales públicas en cualquier caso no va a tener efecto en la situación laboral de los trabajadores públicos la situación en el sector privado es muy diferente el descenso de la actividad ha provocado una pérdida de facturación muy importante y el parón ha tenido efectos negativos en términos de empleo

y entre los trabajadores autónomos ha habido muchos trabajadores

y se han producido importantes caídas de las afiliaciones a la seguridad social

las actividades más afectadas han sido aquellas que se desarrollan con presencia de público como son las artes escénicas

el teatro de calle los conciertos de música las salas de cine o las salas de música son los sectores más débiles en esta situación y los que mayor apoyo van a necesitar la incidencia ha sido menor en las empresas de mayor tamaño y en aquellas dedicadas a la producción audiovisual o el consumo en plataformas digitales de lectura y audiovisuales en resumen quien es en peor situación se encuentran son los agentes profesionales privados

y los autónomos y contratados intermitentes de las artes escénicas

son también quienes peores perspectivas tienen para los próximos meses y a quienes deberemos prestar mayor atención

y la dificultad de encajar su situación en los criterios con los que trabajan las instituciones es una dificultad añadida para abordar las políticas de ayuda en algunos casos

de aprobar dentro de la competencia que les corresponde en el ámbito de las prestaciones de desempleo el anuncio de aprobar por un lado la prórroga del subsidio que cobraron en mayo pasado los artistas de espectáculos públicos así como la aprobación de un subsidio excepcional por desempleo destinado al mundo de los técnicos

por nuestra parte seguiremos en contacto con los representantes del mundo de la cultura con el objetivo de fomentar la actividad cultural y diseñar nuevas líneas de apoyo

angulo jauna zurea da hitza bertatik bueno yo he hecho un corta y pega de la pregunta

que había mandado y bueno no ha sido la respuesta porque

en el artículo hablaba de que la cultura no debería recibir una respuesta especial en esta crisis para nosotros esto no es así

sí sí tiene que estar en un cajón parte porque los valores

otra actividad industrial no no voy a menospreciar las ayudas que desde el gobierno vasco se están dando a la cultura y bueno no han sido pocas también pero

y podían haber sido ayudas complementarias como ya se dijo en su momento también

para las artes en vivo pero también han sido solo cinco días los que han tenido los artistas para poder apuntarse a ese nuevo circuito

está siendo una crisis larga y mientras dure la pandemia vamos a tener momentos valle y momentos pico

no por quienes la conforman sino por el resultado de su trabajo y también

elegir entre unas y otras sino que aprovechemos las oportunidades financieras que en este momento se nos están brindando para revisar las políticas culturales

dar apoyo a la reanudación de su actividad

señor angulo no quiero polemizar pero simplemente le recuerdo

es considera suficientes las medidas adoptadas por el gobierno vasco para el sector cultural ante la actual crisis económica consecuencia de la pandemia gracias

gracias señora presidenta consejeros señorías buenos días

que le hago porque me parece muy interesante y porque me parece muy concreta

algunas referencias y algunas claves han cambiado las cosas usted sabrá que este debate ya lo han tenido también en la cámara y que se han hablado de estas cuestiones pero bueno

han pasado muchas cosas desde el dos mil diecinueve y sí que es cierto que aquí

vamos a tratar de valorar y de recordar no me quiero extender mucho porque me gustaría saber su opinión y es lo de lo que se trata

hay una exclusión de las oficinas de farmacia de la orden del programa de apoyo a la modernización de los establecimientos comerciales

hemos hablado de este tema y el gobierno la verdad es que en anteriores intervenciones no ha logrado convencernos de esa exclusión

existe ahora una nueva situación me refiero a la que vivimos todos pero también existe

un nuevo consejero y más prioridades y más actuaciones en lo comercial también en lo que afecta además a la forma de actuar comercial

pero algunas condiciones han cambiado y han cambiado mucho la situación sanitaria ahí está y hasta hoy

las oficinas de farmacia además incrementadas con su permanente disposición a la colaboración colaboración entre colegios entre las propias oficinas entre la administración esa colaboración

profesional en este país con sus prestaciones comerciales además incrementadas por la situación que vivimos y por los nuevos retos futuros de las oficinas de farmacia me referiré brevemente sin ir más lejos el papel de las farmacias como comercios en la propia implantación de la receta entre países europeos que se va implantando ya en algunos y que según informaciones que vienen del ministerio

se pretende que españa esté también dentro de esa posibilidad ahí las oficinas de farmacia van a jugar un papel esencial como lo están jugando ahora con la receta electrónica que se ha implantado y que ha afectado a las comunidades autónomas y que ahora

interoperable en veintidós países de la unión europea es lo que se pretende esto va a intensificar el papel

en este caso con los ciudadanos de otros países de la unión europea que nos visiten

ir a un establecimiento comercial de estas características y como decía prevista para españa en dos mil veintidós es posible que haya algún retraso

prioridades sanitarias pero es un plan que ahí está porque

a cabo eso va a exigir reformas adaptaciones digitales informáticas importantes como exigió la receta electrónica española como lo exige el día a día

oficinas de farmacia ahora se va a ampliar también la

a exigir también nuevos programas informáticos o a adaptación de los que ya tienen exigencias

pública que cada día van cambiando y se tienen que ir implementando actualizaciones constantes en estos procesos digitales telemáticos verificación de medicamentos por su calidad un elemento fundamental de cara al usuario al cliente de la farmacia y a la verificación uno de los grandes temas de la farmacia al almacenamiento y a la robotización

a nuevas fórmulas de comercialización pues ahí están los elementos importantes

actividad comercial y del contacto de los farmacéuticos con sus clientes que somos todos nosotros es decir la farmacia es comercio de proximidad lo es

paradigmático ejemplar un centro también de salud efectivamente o un centro incluso sociosanitarios por lo del consejo por muchas de las cuestiones

que afectan a la actividad diaria del farmacéutico también es un centro privado de interés público es una referencia también en núcleos rurales en relación con el contacto

y no entendemos y eso es lo fundamental seguimos sin entender esperemos que usted señor

no entendemos cómo se les priva de las ayudas del departamento de comercio

incomprensible rechazo por eso a la vista de que el artículo tres

dos mil veinte de la consejera su predecesora de turismo comercio y consumo por la que se regula y convoca para el ejercicio dos mil veinte el programa de apoyo

factor afecta de una manera especial a estos establecimientos comerciales que son las farmacias

dice que no serán beneficiarias de las ayudas reguladas entre otras epígrafe farmacias comercio al por menor de medicamentos productos sanitarios e higiene personal

no lo entendemos en momentos como ese y por eso señor consejero cuál es el propósito del gobierno vasco en relación con esto que le acabo de exponer muchas gracias eskerrik asko

vuelve usted a trasladar de nuevo a esta cámara la exclusión de las oficinas de farmacia de las órdenes que convocan el programa en este caso la de modernización de establecimientos comerciales

y posteriormente presentó una moción de la cual en el pleno en la que debatió se escucharon distintos argumentos pero con un

generada por el covid diecinueve y el impacto negativo que está teniendo en el sector que represento

no podemos olvidar las imágenes de nuestros comercios cerrados por las medidas de seguridad que se adoptaron y que tanto daño han hecho a este sector que sigue luchando y va a seguir luchando por salir adelante entrando en la materia efectivamente usted se refiere a uno

el que usted menciona son cinco y le puedo asegurar que esas exclusiones se deben a fundamentos

el plan estratégico de turismo comercio y consumo dos mil diecisiete dos mil veinte contiene un apartado específico el plan director de comercio

las políticas a aplicar y las prioridades establecidas para las ayudas al sector y las razones para considerar a las oficinas de farmacia diferentes a los establecimientos comerciales generales

por un lado la normativa de aplicación y la propia caracterización del establecimiento y segundo la situación económica o la afectación de la crisis la normativa básica que afecta a las oficina de farmacias es la ley once barra noventa y cuatro de diecisiete de junio de ordenación farmacéutica de la comunidad autónoma del país vasco

distribución de los establecimientos para ello se establecen las zonas farmacéuticas por criterios técnicos sanitarios que son los que fijan el número de oficinas de farmacia por demarcación y número de habitantes esta es una diferencia básica y radical entre un tipo de establecimiento y otro pero hay más

a las nuevas circunstancias que van generándose voy a recordarle lo que ya le transmitió la anterior consejera de salud nekane murga el

entre el departamento de salud y los colegios oficiales de farmacéuticos y que ha tenido como resultado diversos convenios que salen fórmulas y condiciones para distintos tratamientos

labilidad económica comprometida con una serie de datos objetivos fijan

en los debates precedentes se puso sobre la mesa el esfuerzo de las oficinas de farmacia para incorporar la

habría que señalar que para ello las aproximadamente cuatrocientos ochenta oficinas de farmacia recibieron dos millónes de euros que tiene una incidencia relativa mayor que el propio programa de ayudas de modernización

de la normativa específica que regula las oficinas de farmacia y la consecuente caracterización especial se derivan elementos que muestran las diferencias entre los establecimientos de comercio y esto y que tiene repercusión en su situación económica y en estos momentos también por la afectación de la crisis

dado que el número de ellas no está en función de la iniciativa privada sino que es la ley de ordenación farmaceútica la que rige las condiciones para su apertura

de otros y puesto que la ley tiene entre sus objetivos que el medicamento se dispense con las debidas garantías de control y de información al usuario

que son considerados profesionales sanitarios técnicos del medicamento

tampoco debemos olvidar que el cuerpo de actividad de las oficinas de farmacia es la dispensación correcta de los medicamentos y no la venta de otros productos

pues bien estas diferencias son las que han tenido en cuenta a la hora de emitir las últimas órdenes que han regulado y convocado los programas de apoyo a la modernización de establecimientos comerciales esta decisión

de turismo comercio y consumo de euskadi en el que se incluye el plan director de comercio que entre todas las iniciativas y programas incorpora esta ayuda de modernización de establecimientos comerciales

se califica este como programa dirigido al sector comercial en general para promover la modernización y la competitividad

en el mismo apartado se establece que este programa ha de recoger las medidas destinadas a priorizar epígrafes y zonas en las que se considere más necesario incentivar y proveer las inversiones destinadas a la renovación y modernización de sus equipamientos incentivando las inversiones ligadas a planes de viabilidad y a favorecer la modernización tecnológica del comercio minorista me consta señoría que cuando se incluyó el epígrafe el seis mil quinientos veintinueve de farmacias

se ha tenido en cuenta que la modernización tecnológica se había dado en las oficinas de farmacia a raíz de la implantación de esa receta electrónica

de viabilidad de las farmacias ya tiene su soporte porque cuando hubo que priorizar se hizo con el tipo del comercio que se consideraba más vulnerable por la situación económica y con más necesidades de adaptación tecnológica

el sector minorista urbano se consideró como prioritario dada la importancia que tiene para nuestros municipios y barrios un tejido comercial renovado y competitivo espero

razonables meditados y contrastados y que responden a una necesidad de priorizar el destino de las ayudas públicas

por último permítame también volver a reiterar mi más rotundo apoyo

como servicio esencial que garantiza a la ciudadanía una adecuada y homogénea atención farmacéutica y una disposición de medicamentos efectiva con un precio justo y una calidad aceptada y segura y coincido con muchas de las manifestaciones que usted ha hecho sobre su papel esencial sobre el esfuerzo de la tarjeta electrónica

establecimientos pero creo que he respondido a fondo a la cuestión de la diferenciación

consejero bueno vemos que se mantiene desde luego ese criterio restrictivo precisamente en un momento como este de la relevancia del papel de las farmacias de la importancia la necesidad de ser

una actividad comercial básica por qué durante años han estado integradas en esas ayudas me puede decir que

cada día las cuestiones de verificación de medicamentos pues para la calidad

de receta electrónica en el ámbito de la unión europea y de sus necesidades se van a incrementar es decir es posible que haya que buscar otra ubicación de esas ayudas otro nombre incluso otro departamento en el que ubicarlos pero bueno usted forma parte de un órgano colegiado que es el consejo de gobierno y lo que tenemos que dar salida es a la actuación a la actividad de estos establecimientos comerciales

muy fríos señor consejero estamos hablando de una dimensión comercial comercio reglado de proximidad y desde luego no se pueden mezclar eso con otras dimensiones que tiene también la oficina de farmacia y los farmacéuticos usted ha hablado de convenios sí convenios de salud

profesionales de farmacéuticos con osakidetza con el departamento de salud sí y eso tiene una dimensión

tiene que implementar determinadas actuaciones en las oficinas de farmacia es muy común en otros países en otros países vacunan incluso o hacen las pcr y bueno pues todavía no pero es un comercio que tiene que estar siempre dinámico preparado muchas claves y en las de salud lo está

y si hay un plan director de comercio algo se podrá hacer será un plan dinámico pero la función comercial está ahí lo hemos dicho en algunos momentos es posible que sí que se hayan llevado en algún momento

de las ayudas al comercio establecidas en las órdenes de ayuda pero bueno se amplían a esas ayudas o se

para este tipo de actividades comerciales no pero desde luego

sufriendo desde luego también las consecuencias de la crisis y en este caso pues van a tener desde luego muchos más gastos que hacer inversiones que hacer mire en euskadi es ejemplar además la situación de las oficinas de farmacia el número de farmacéuticos por farmacia

de media o sea superior al conjunto de españa por supuesto dos coma cuatro pero superior al conjunto de los países de la unión europea de los más ricos o sea que en ese sentido esas ochocientos treinta y cuatro oficinas de farmacia vuelvo a decir que igual ahora son algunas más o alguna menos no sédatos de dos mil diecinueve esas

elaboran permanentemente un esfuerzo de profesionalidad y laboral

en la calidad como establecimiento comercial que son no mire además

mire además de la función estrictamente de salud y de la función reglada

que le pone la ley de ordenación farmacéutica tenemos que hablar de que son comercios puros y duros es decir cosmética segura alimentación infantil

cuidados del bebé podología homeopatía parafarmacia

son establecimientos comerciales que tienen sus clientes pues como

son un ejemplo de establecimiento comercial

yo creo que tenemos que llegar en esta legislatura a un acuerdo para que haya algún tipo de establecimiento o de órdenes de ayuda porque su papel

va a ser relevante vuelvo a decir que entiendo que

alguien haya podido influir en haberlas sacado hace tres años de ese plan de ayudas pero

de la modernización hasta ahora no es una modernización que sigue y que a partir de ahora igual es todavía más relevante que la que tiene ahora muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

señor barrio bueno voy a hacer una reflexión y le voy a reconocer

de esta semana que usted ha planteado yo he escuchado al departamento he escuchado los razonamientos he leído la orden he leído la interpelación que usted hizo he leído la moción de hecho

igual de hecho no ha actualizado los datos del dos mil diecinueve que comentó la otra vez

cuál era la motivación de volver a traer hoy este mismo asunto

razones de que hayan cambiado en base a los criterios que le he dicho es más durante el estado de alarma

siendo servicios esenciales no creo que sea la razón

coloquial pero que ya me ha pasado algunas veces bueno pues en el congreso de los diputados con el asunto de los controladores un ilustre

era por un familiar una cercanía a una persona del sector

también legítima entiendo que no y la otra que quiera enfrentar usted a este sector a este departamento

comparto la valoración que hace usted de que la importancia que tiene y de todo lo que hemos hecho bueno yo creo que más o menos lo ha contestado usted en la segunda intervención usted ha probado ha dicho ha cambiado la consejera de salud ha cambiado el consejero de a ver si cambian el criterio del departamento bueno pues el criterio del departamento está arreglado está explicado

y vamos a mantener pero bueno yo también he pedido la información de sus preguntas

un gran número de preguntas sobre este sector en esta acabamos de empezar

le diré que vamos a elaborar un nuevo plan de comercio hostelería y una estrategia global de turismo y comercio bueno y trasladaré que esta reflexión la volvamos a hacer

que los criterios son los mismos están bien explicados están bien detallados y la decisión es correcta pero como todo